esta iniciativa tiene su origen en un acuerdo de esta cámara en la que se acordó constituir una ponencia de estudio con el fin de analizar el contenido fines y responsabilidades de un posible fondo de compensación del amianto dentro del contexto europeo

en términos de propuestas con el fin de que sus recomendaciones puedan incorporarse a la estrategia vasca de salud laboral de esto ya hace

por lo tanto nos ha llevado un tiempo avanzar en este aspecto desde el grupo popular seguimos firmes en la idea

en esta cámara aprobamos el informe de ponencia en el informe de ponencia si ustedes recuerdan este era el acuerdo mayoritario al que llegamos

en la ponencia muchos de los ponentes expusieron asociación de afectados del amianto a quien quiero darles la bienvenida a esta cámara agradecerles su presencia y valorar el trabajo y la constancia de los afectados que han hecho que hoy estemos ante este acuerdo

como decía que ese fondo debe ir más allá del ámbito de la comunidad autónoma ese fue el acuerdo de la ponencia

del gobierno central pensando en que lo ideal sería un fondo de ámbito europeo de equiparación para todos los afectados por el amianto en la unión europea pero vamos paso a paso vamos avanzando no sé si con la celeridad necesaria pero sí dando pasos firmes de igual manera

desde el grupo popular firmes en este aspecto insistimos en la necesidad de abordar otros ámbitos y actuaciones que dentro de nuestra comunidad autónoma son necesarios aplicar para aliviar la situación que padecen los afectados por el amianto y que se pusieron de manifiesto en la ponencia esta cámara no a una iniciativa que presentamos pero no renunciamos a seguir insistiendo en lo que creemos necesario y así lo seguiremos haciendo sabemos que la constancia el trabajo y el sentido común tienen y su éxito por lo tanto seguiremos insistiendo nada más muchas gracias

egun on lehendakari señorías en primer lugar decir que

es para ellos y para otros que como ellos padecen esta problemática para lo que se ha hecho este trabajo en segundo lugar y aprovechando la circunstancia

y decir que bueno como grupo que propuso en su momento la creación de la ponencia debemos de expresar nuestra satisfacción por el trabajo realizado y decir también en términos más personales e intimistas que seguramente de todos los acuerdos en los que este parlamentario ha participado es el que más satisfacción me causa por lo que ha dicho

profuso se ha prolongado en el tiempo todavía recuerdo cuando en la legislatura anterior se creó también la ponencia a través de un debate que planteaba otras cosas o parecidas y entonces cuando se planteó la creación de la ponencia surgieron lógicamente las opiniones al uso pues en fin no hay nada imposible salgo que caiga en manos de una ponencia esto es una manera de echar balones fuera

demuestra que cuando hay voluntad las ponencias o cualquier otro órgano de trabajo de esta cámara

solo nos podemos felicitar por el trabajo realizado esperar que ahora mediante la iniciativa legislativa ante cortes pues este texto como moisés en el nilo se ha recogido en su momento

con el interés que merece y termine dando lugar a un texto que se nos homologue con los demás países desarrollados que tienen un fondo de esta naturaleza para

un especial saludo hoy también a los representantes de la asociación de afectados por el amianto que hoy nos acompañan eskerrik asko

hace dos semanas pasé unas horas con jose mari y marisa les conozco

trabajó muchos años en una empresa que fabricaba el ferodo de los frenos y los embragues marisa lavaba sistemáticamente su ropa de trabajo jose mari está afectado por amianto

durante nuestra conversación me hicieron fundamentalmente tres preguntas qué se puede hacer en esto del amianto qué se está haciendo realmente

yo tengo la oportunidad de convertir sus preguntas en el guión de esta intervención

se puede hacer prevención de la exposición se puede hacer vigilancia en la salud y se puede hacer compensación y qué se está haciendo

de retirada por empresas autorizadas y se trasladan a depósitos controlados

de los trabajadores expuestos con la información de su historia clínica como ciudadanos lo que conlleva un conocimiento más sistemático de los posibles daños

específicos para vigilar la posible aparición de patologías relacionadas con la exposición se está gestionando y actualizando el fichero de las personas trabajadoras expuestas a amianto

este es el objetivo del debate de hoy es también el objetivo que persigue la ponencia y este es el objetivo o el objeto de la tercera de las preguntas la más concreta de jose mari y marisa qué se va aprobar hoy en el parlamento

sufridos por los trabajadores basados en la demostración de existencia de culpa por parte del empresario en el marco de una demanda civil por daños y perjuicios desde principios del siglo veinte se impusieron los sistemas de compensación sin culpa

por el solo hecho de haber sufrido un daño en el trabajo haya o no culpa del empresario al que se considera responsable a este al empresario objetivo del daño en estos sistemas que han prevalecido hasta nuestros días

generalmente por obligación legal por el empresario estos sistemas de compensación sin culpa eficaces cuando el daño

de inmediato y la relación de causa efecto entre el trabajo y el daño suele ser obvia lo son mucho menos en el caso de las enfermedades profesionales en las que es frecuente que la enfermedad se manifieste bastante tiempo después

el caso del amianto es particularmente complejo en primer lugar el tiempo de latencia entre la exposición y la aparición de la enfermedad

en segundo lugar un número de casos relativamente elevados alrededor de un veinte por ciento se produce en personas que no han estado expuestas profesionalmente al amianto como marisa

siendo la causa de la exposición la contaminación ambiental en muchas ocasiones que en cantidad de casos no tiene un culpable definido en tercer lugar el número de afectados es relativamente elevado muy elevado es por ello

suelen manifestarse inoperantes por lo que los afectados se ven obligados a recurrir a los tribunales para lograr el resarcimiento al que consideran tener derecho

en algunos casos no haya empresa a la que reclamar en otros muchos afectados no consiguen ver vivos así de duro

por todo ello la mayor parte de los estados de nuestro entorno que han tenido los mismo niveles de utilización de amianto

a las víctimas del amianto en el estado español no va tarde quince años tarde como ya expusimos en el pleno del quince de marzo injustificadamente tarde irresponsablemente tarde y lo que es peor no hay ningún indicio

de intentar corregir esta situación la ponencia en este parlamento se constituyó con el objetivo de estudiar la posible creación de un fondo de estas características su conclusión principal es clara necesidad de creación en el estado de ese fondo de compensación

y para materializar esta conclusión y después de haber analizado detalladamente todos los modelos de fondos en funcionamiento en europa creemos adecuado seguir un modelo similar

por lo que incluimos en nuestra propuesta un texto articulado que lo estructura

cuando se aprueba una proposición no de ley que se le ponen deberes a un gobierno hoy no aprobaremos una proposición no de ley aprobaremos esta proposición de ley

que el estado español de manera incomprensible no ha hecho

y lo hacemos desde la unidad el acuerdo unánime y el convencimiento de que estas personas las víctimas y sus familias merecen compensación

en los tribunales es hora ya de reparar todo el daño que han sufrido es de justicia eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna

sí gracias presidenta buenos días a todas y a todos señor consejero

recordaba en la justificación de su iniciativa que la ley de vivienda

reconoce el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada y que las administraciones públicas vascas competentes podrán dar cumplimiento a ese derecho de acceso ofreciendo en alquiler una vivienda protegida

con la renta o canon apropiado para cada caso y en caso de no disponer de vivienda o alojamiento y con carácter subsidiario ofreciendo una prestación

existe la prestación complementaria de vivienda que serviría para que los ciudadanos con

con la vivienda y apuntaba eh bildu que la segunda disposición adicional de la ley no concreta cómo se integrarán la ya existente prestación complementaria de vivienda

señalaba eh bildu que estas dudas fueron aclaradas por la ley de presupuestos cuya séptima disposición adicional recoge que el régimen previsto para la prestación complementaria estaría en vigor hasta que las disposiciones reglamentarias previstas en la ley de vivienda sobre la implantación de un sistema de prestaciones económicas

de ese modo cuando se encuentren en vigor las disposiciones reglamentarias de la ley no se reconocerán más prestaciones complementarias de vivienda esto es lo que la proposición de ley de eh bildu quería modificar de modo que ambas prestaciones convivan y sean complementarias aunque

que plantea ni el hecho de que se plantee modificar una ley aprobada recientemente aprobada hace apenas once meses y después de largos meses de debate no compartimos esta modificación que plantea eh bildu asunto que consideramos zanjado con la aprobación de la ley de vivienda que no lleva ni un año en vigor y también con la transaccional aprobada

que fue firmada por el grupo socialista y un servidor por lo tanto este asunto pensamos que ya fue

perfectamente aclarado podemos recordar en todo caso qué es lo que decía aquella transaccional que firmamos el grupo socialista y upyd y que fue aprobada por este parlamento hace apenas un mes instábamos al gobierno

a la ocupación legal estable de una vivienda digna y adecuada a aquellas personas que carecen de los recursos económicos precisos para conseguir una y subsidiariamente mediante prestaciones

ni los desarrollos reglamentarios de la ley podrán suponer ni en requisitos ni en cuantías ningún recorte en los derechos reconocidos hasta el presente

la confluencia e integración de la prestación complementaria de vivienda y de la nueva prestación económica de vivienda prevista no la mera sustitución de una por otra

en las viviendas pertenecientes al parque público de alquiler gestionadas por el gobierno frente a la asignación de una prestación económica

a que el decreto de desarrollo del derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada establezca tres años como antigüedad máxima en la condición de demandante

que en ningún caso los requisitos sobre la renta exigible a los beneficiarios del derecho subjetivo a una vivienda digna puedan ser superiores a los señalados en la ley de garantía de ingresos y para la inclusión social para la obtención de la rgi

que tiene que vaya a tener o que haya tenido esta ley de vivienda en la sociedad vasca y finalmente que en el plazo de tres meses desarrolle un plan para que las viviendas propiedad del gobierno que lleven más de un año vacías sean destinadas al alquiler social por lo tanto consideramos que este es

perfectamente zanjado no se trata de modificar ahora la ley once meses después sino de cumplirla estrictamente y cumplir también que el gobierno cumpla el contenido de la transaccional que firmamos hace escasamente un mes por lo tanto yo creo que el objetivo es que

ambas prestaciones económicas tanto la prestación complementaria de vivienda como la prestación económica recogida en la ley de vivienda que confluyan ambas y que en ningún caso se produzca ningún recorte como digo pensamos que este es un asunto zanjado y no es buena idea tratar de modificar una ley

de haber sido aprobada por lo tanto lo que hacemos es instar al gobierno al cumplimiento estricto de la ley y al cumplimiento también de la transaccional aprobada por este parlamento

sobre la ley de vivienda y como dije la última vez que lo debatimos y quiero reiterarlo hoy aquí lo que te rondaré morena porque hemos dicho en muchas ocasiones

pero no cualquier ley de vivienda y la que resultó aprobada en esta cámara era una mala ley lo quiero volver a repetir era una muy mala ley

las iniciativas que al respecto se están haciendo para intentar mejorar los errores que tenía una ley como he dicho en muchas ocasiones

y de lemas con muchas expectativas que pueden verse frustradas y no querer esta ley decir que esta ley es mala no es decir que no queremos que se garantice

no se garantiza porque no es suficiente que se reconozca el derecho subjetivo sino que es necesario tener

y tal es así que la propia ley viene a decir que la satisfacción del derecho no se hará para todos en un primer momento sino que se hará de forma escalonada y que ante la falta

la proporcionar una vivienda por una prestación económica prestación económica cuyos requisitos vienen establecidos en la propia ley si no se está de acuerdo con esos requisitos no debiera de haberse aprobado esa ley pero en esa ley aparecía cuáles eran los requisitos que tenía que tener esa prestación y además también en los presupuestos para el ejercicio dos mil dieciséis en esa ley en una disposición se establece cual es el importe luego si el importe no es suficiente tampoco debieran de haberse dado el apoyo a esos presupuestos pues bien

en el que se debatió la ley de vivienda ya este grupo y otros grupos pusimos de manifiesto la contradicción que se iba a producir porque iban a convivir al mismo tiempo dos prestaciones la prestación complementaria de vivienda y la prestación regulada por la propia ley y que tenían requisitos diferentes pero además

es que esa prestación complementaria de vivienda tiene que desaparecer y tiene que ser sustituido por ese derecho subjetivo a la vivienda y en caso de no tener viviendas como decía

económica y lo que se pretende con la iniciativa es que se perduren en el tiempo las dos prestaciones lo que se pretende con la iniciativa es que lo que se concibió desde un primer momento el que es la prestación complementaria de vivienda como una medida

se desarrollasen las políticas de viviendas que permitiesen garantizar a los ciudadanos una vivienda digna y adecuada se convierta en definitiva es decir que haya dos perceptores por una parte los perceptores los que tienen

cuando creo que la propia concepción de la prestación complementaria de vivienda nunca nunca se concibió así por lo tanto creemos que lo que se persigue con esta ley además de ser algo que ningún momento

que es mantener en el tiempo de manera indefinida la prestación complementaria de vivienda tampoco consigue los objetivos porque ha hablado el proponente

económica sea suficiente pero eso no se consigue con esta ley eso no se consigue con esta ley eso se consigue

establezca que esa prestación complementaria que viene a sustituir esa vivienda que se tiene que poner a disposición de los ciudadanos sea suficiente sea suficiente no se consigue

en el tiempo esas dos prestaciones de vivienda por ello este grupo ha votado en contra porque como decía esta ley es una mala ley es una ley que nació con mucha inseguridad jurídica y que pretende trasladar esa inseguridad jurídica ahora con la modificación planteada por el grupo eh bildu creemos creemos que lo debiera hacerse es desde luego

de esta ley de vivienda y aprobar una ley de vivienda que garantice el acceso que todos los vascos tienen a una vivienda digna y adecuada pero desde una posición
realista y sin populismos nada más muchas gracias eskerrik asko llanos

gracias presidenta bueno explicación de voto nosotros como

y la explicación que debemos dar es la siguiente no podíamos votar en contra naturalmente de su proposición porque no olvidamos que ustedes tomaron en consideración la nuestra en su momento y fueron una pieza nuclear junto con unión progreso y democracia y nuestro propio grupo para alumbrar la ley pero tampoco podíamos votar a favor

lo creemos sinceramente en la justificación de su proposición de la misma manera que en la explicación que ha dado aquí se basan en la idea de que efectivamente

conducen según su parecer a la necesidad o a la exigencia de hacer esa modificación nosotros creemos que no es un argumento suficiente porque el gobierno con voluntad o sin ella tendrá que cumplir la ley otra cosa que es verdad estando en la posición regia que ocupa pueda hacer interpretaciones forzadas

o puede hacer interpretaciones no acordes al espíritu de la ley eso es verdad hasta tal punto de que si bien el gobierno en su página de irekia dice que no considera razonable hacer modificaciones el mismo día que no tomaba en consideración la misma los titulares de prensa decían todo lo contrario por tanto es difícil saber por dónde va

lo que nosotros creemos es que se ha creado un problema artificial con ese borrador de decreto que por cierto no es nueva normativa no se está aplicando se está aplicando como dice la ley de presupuestos el criterio anterior el de la pcv el que tiene requisitos y condiciones de acceso más favorables que el que plantea la disposición transitoria que como se ha recordado hace un momento

que no era necesario que no veíamos para nada justificado hacer modificaciones porque de entrada lo que hace es dar la razón a todos los que se oponen a ella a todos aquellos que consagran el principio de la propiedad como un derecho absoluto sobre todas las cosas para ellos sí es efectivamente una mala ley

nosotros creemos que la ley dista mucho de ser perfecta como cualquier creación humana

las modificaciones oportunas ustedes lo planteaban en términos de urgencia en términos

modificación exprés si hubiera sido así ya lo dijimos en su momento no nos habríamos opuesto pero realmente esto requería consensos que no se dan y por lo tanto va a dar lugar

como ya conocen para la modificación y supongo que de paso habrá más de un grupo que querrá introducir otros elementos por supuesto esta legislatura que está en el tramo final ya le queda poco que poder aportar a todas estas cuestiones supongo que en la próxima legislatura con otras mayorías con otros

presupuestos políticos quizás pueda llevarse a cabo esta propuesta y otras muchas que mejoren la ley sin duda lo que nosotros creemos es que

tiene mucho recorrido por hacer tiene toda una serie de reglamentos que se pueden llevar a cabo sin menoscabar para nada los derechos adquiridos y siendo fieles y leales al espíritu de la ley

ni nos hemos opuesto ni hemos votado a favor eskerrik asko itxaso jauna euzko abertzaleak aldaiturriaga jauna zurea da hitza

erabat zentzuzkoak direlako las razones que manifiesta el gobierno son resumidamente las siguientes

dado de que la situación que pretende regular ya se halla resuelta

para satisfacer una misma necesidad social máxime cuando una de ellas la primera se estableció con carácter transitorio hasta la entrada en vigor de la otra

entre los órganos gestores de ambas prestaciones no resuelve por sí mismo la problemática

pero no solo hacemos nuestras las razones del gobierno sino que además añadiremos algunas otras propias de nuestro grupo en primer lugar diremos que sobre el asunto de la relación entre la pcv y el derecho subjetivo de vivienda

no es la segunda parte del debate que tuvimos hace un mes como ya se ha explicado y a ellas me remito bildu nos presenta una proposición de ley que a nuestro juicio carece del más elemental sentido común pues no explica las razones que justifican su propuesta

nos propone establecer una regulación del asunto de la existencia de estas dos prestaciones de un modo que ya se encuentra establecido en nuestro ordenamiento jurídico

al parecer el proponente pretende que la prestación complementaria para gastos de vivienda se mantenga y sea incompatible con el derecho subjetivo de vivienda

existentes en euskadi para materializar el derecho de acceso a una vivienda

a pesar de la ausencia de análisis nos presenta una propuesta a su juicio rotundísima y nos propone

mantener los dos derechos subjetivos tal cual se hayan regulados que la gestión del derecho subjetivo

y que corresponda al departamento de empleo la competencia para gestionar la pcv seguramente creo que los proponentes no han realizado una lectura sosegada de la ley de vivienda

porque esta propuesta no aporta absolutamente nada a la solución del problema que plantean que consiste en eliminar la situación de riesgo derivada

en la solución propuesta por bildu entendemos que es más estética que analítica

poner de manifiesto la ligereza con que se analizaron y se aprobaron en esta cámara hace menos de un año algunas de las cuestiones fundamentales de la política de vivienda contenida en la citada ley de vivienda

ni siquiera en su vertiente económica y con esta proposición se sigue en la misma línea de no aportar argumentos y realizar propuestas que no tienen más base que la pura ocurrencia estamos de acuerdo con el grupo proponente

y del derecho subjetivo de vivienda pero también eso lo dijimos nosotros anteriormente

en este pleno nuestra postura al respecto se halla recogida en los diarios de sesiones y el que esté interesado que acuda a ellos para resolver el problema de fondo

fue necesario establecer una previsión legislativa concretamente la recogida en la disposición adicional séptima

se ha establecido un régimen transitorio en el que se garantiza la vigencia de la pcv hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario del derecho subjetivo de vivienda en consecuencia con la regulación efectuada

no se elimina o reduce ningún derecho de los titulares de la pcv

y por tanto tampoco acierta bildu con la fórmula pretendida al pretender valga la redundancia de que el derecho subjetivo de vivienda

porque desconoce la propia estructura administrativa de la comunidad autónoma por tanto como todo el mundo sabe en el gobierno no existen dos departamentos diferenciados sino solo uno el departamento de empleo y políticas sociales creado en el año dos mil doce por el lehendakari y el que se le atribuye

y el que las ayudas las gestione una u otra unidad administrativa dentro de un mismo departamento es irrelevante lo importante es la regulación sustantiva en definitiva que la situación que bildu pretende regular ya se halla resuelta y a su proposición señor maeztu a pesar de que no está aquí en estos momentos sí perdona no lo veía a pesar le decía que la proposición que le falta tanto acierto en la solución propuesta como le sobra demagogia en su discurso beraz

egun on denoi señorías se huelen las elecciones

solo algo así puede explicar que el gobierno se haya venido a reconocer lo que algunos venimos repitiendo con tanto esfuerzo cómo el ejecutivo se empeña en disimular que quien tanto reivindica el autogobierno no sabe usar el autogobierno

si realmente supiera la gran capacidad que tiene para actuar con sus propias competencias

no hubiera hecho falta ya nos habría llegado un proyecto de ley para su tramitación urgente y por lectura única en esta cámara los grupos hemos dado muestras de nuestra responsabilidad especialmente los socialistas y hubiéramos facilitado la aprobación de esta ley

desde que el gobierno de rajoy que todavía no estaba en funciones nos lanzó el último de sus decretazos es decir

un decreto que los profesionales a través de la mesa de la profesión enfermera definieron como un texto que supone una traición sin precedentes en la historia de la democracia

y alevosía por el procedimiento de a habla con b b habla con cien cien habla con rajoy rajoy habla con el ministro

este decreto que esos mismos profesionales dijeron que va en contra de los intereses de los pacientes de la realidad sanitaria y del sentido común

respondió como es su costumbre echando balones fuera y sin asumir qué se puede hacer con nuestras propias competencias desde euskadi el consejero como mucho aspaviento mucha invasión desde madrid mucho reconocimiento de la profesión y anunciar un recurso que fue el último de todos los que se han presentado por las diferentes comunidades autónomas mientras otros la oposición le reclamábamos actuar le decíamos

el vacío que dejaba el decretazo y de ahí su respuesta de lo estamos estudiando hay problemas y dudas y una instrucción

que generó y que permitió un incremento de tensión entre los diferentes profesionales concernidos hoy

entre médicos y profesionales de la enfermería es decir balones fuera nada resolutivo la oposición en cambio desde el minuto uno desde que conocimos la aprobación del decreto trabajamos para

que su preparación y capacitación actual les permitiría realizar

eh bildu en este sentido estuvimos los socialistas y eh bildu quiso compartir con nosotros también

sin más dilación con una ley que dé seguridad jurídica a la práctica diaria de la enfermería eso es lo que intentamos hacer con nuestra propuesta porque nuestro estatuto

la regulación de las prestaciones sanitarias en este sentido nos permite regular las actuaciones de enfermeros y enfermeras cooperando

de determinados tratamientos con medicamentos también regular su facultad de usar e indicar medicamentos no sujetos a prescripción médica

e indicar y prescribir productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica del sistema sanitario de la comunidad autónoma del país vasco esto es

en las que deben prestar sus funciones los enfermeros y enfermeras como siempre cooperando en el seguimiento protocolizado de determinados tratamientos con medicamentos y décimos bien en cooperación los profesionales de la enfermería no pretenden suplir al médico nunca lo han hecho

supla las competencias del médico es el médico quien debe realizar el diagnóstico y fijar el tratamiento pero tal y como se ha explicado el decreto de diciembre impide realizar tareas tan habituales como la cura de ulcera con pomadas la vacunación de los niños en los colegios

regular estas funciones es algo que si podemos hacerlo hoy

podíamos haberlo tenido previsto durante todo el año pasado mientras se elaboraba el decreto y se encendieron las alertas hubiéramos podido hacerlo pero el gobierno no lo hizo se cruzó de brazos y cuidado que tiene antecedentes bien conocidos cuidado que ya sabíamos cómo se las gasta rajoy

desde luego los socialistas lo teníamos bien presente véase el decreto dieciséis barra dos mil doce el denominado de los recortes sanitarios que

en lo relativo a servicios sociales a derechos la diferencia es que aquel gobierno que les precedió

siempre ofreció respuestas para paliar estos ataques el real decreto dieciséis barra dos mil doce de recortes sanitarios fue respondido por el

evitando recortes hasta que el tribunal constitucional lo suspendió parcialmente en lo referido al copago asunto que todavía no ha sido resuelto por el tribunal constitucional desde entonces en euskadi ideamos otra fórmula temporal las compensaciones por esos repagos a las familias con menos recursos una fórmula que rechazó con insistencia el pnv y el gobierno de urkullu

porque este gobierno siempre duda de sus propias competencias siempre por eso hemos tomado una vez más la iniciativa no podíamos dejar en manos de este departamento una planificación que hubiera terminado durmiendo el sueño de los justos porque ya hemos visto que todos los planes de este ejecutivo miran al dos mil veinte y no podíamos permitir

y planteamos la proposición que hoy se va a tramitar y queremos que no haya palos en las ruedas para tramitarlo esperamos que desde el grupo que apoya al gobierno no exageren en las peticiones de ampliaciones de plazo no porque no esté en su derecho es porque las enmiendas

sorprendentemente en el criterio emitido a esta cámara figuran las enmiendas que va a hacer que sugiere el propio gobierno

por las que es favorable o por las que es desfavorable no indicando en qué sentido hay que modificar la ley que en cualquier caso es competencia de esta cámara y no del gobierno

que están en este momento en el limbo de la prescripción enfermera y que votan pues bien

a que este descubrimiento repentino de las competencias y del autogobierno se refleje en su actitud en estas pocas semanas que vienen por delante

son las que plantea el criterio del gobierno hace meses que podríamos haber gestionado esta cuestión para traer

o un proyecto por urgencia y de lectura única pudieron hacerlo pero no lo plantearon por eso si ahora ven recorrido en nuestra iniciativa

y que ya que han expresado su voluntad de habilitar fechas en julio para aprobar leyes sobre las que haya posibilidades de acuerdo sino es posible en junio que lo sea en julio

en contra de la iniciativa de la proposición de ley planteada por el partido socialista y eh bildu una proposición

quería como lo hemos hecho en otras ocasiones destacar el papel de la enfermería su papel imprescindible en la sanidad en la sanidad vasca y también en todo el proceso

como es la atención primaria en la recepción pacientes en todo lo que tiene que ver con la promoción y prevención de la salud en la atención especializada

continuidad de cuidados tanto es así

que desde el ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad

acuerdos con el colectivo de enfermería me voy a permitir citar algunos de ellos acuerdos del ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad

en julio de dos mil trece en el marco del pacto por la sanidad recursos humanos y gestión clínica el acuerdo

estatal de profesionales sanitarios mediante el real decreto seiscientos cuarenta barra dos mil catorce de veinticinco de julio también el

de trece de marzo acuerdo en la acreditación de los diplomas de acreditación y acreditación avanzada mediante el real decreto seiscientos treinta y nueve barra dos mil quince del diez de julio

para el establecimiento de los requisitos de acreditación de las unidades docentes multiprofesionales para la formación de especialistas en enfermería familiar y comunitaria mediante

de mayo constitución del foro profesional junto con los médicos en marzo de dos mil quince con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad asistencial

profesiones elaboración también el pasado veintinueve de enero de una guía de bioseguridad para los profesionales sanitarios

en función del real decreto que nos ocupa hoy también el debate en esta cámara

el decreto novecientos cincuenta y cuatro barra dos mil quince de veintitrés de octubre por el que se regula la indicación el uso y la autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros

de una competencia ya prevista en la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y los productos sanitarios y también

uno barra dos mil quince de veinticuatro de julio tenemos que decir como ya lo hemos repetido en reiteradas ocasiones

la capacidad de prescribir medicamentos sujetos a prescripción médica sigue siendo de los médicos odontólogos y podólogos

y en el ámbito de la ley de garantías a la que acabo de hacer referencias y que se han atribuido competencias a los enfermeros

en dos tipos de actuaciones la facultad para de forma autónoma indicar usar y autorizar la dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y productos sanitarios mediante una orden de dispensación y la facultad de indicar usar y autorizar

una vez que se regule la aplicación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial de elaboración conjunta acordados por las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros

nacional de salud esta facultad será objeto de seguimiento por parte del profesional sanitario que haya determinado el protocolo guía clínica de indicación a los efectos de su adecuación al mismo así como de la seguridad del proceso y de la efectividad del tratamiento por lo tanto este real decreto da respuesta demanda histórica de los profesionales y forma parte de los acuerdos por la sostenibilidad y la calidad del sistema nacional de salud suscritos entre el ministerio de sanidad el consejo general de enfermería y el sindicato en julio de dos mil trece que regula tanto la elaboración de protocolos y guías de práctica clínica la acreditación de los profesionales en cuanto a la elaboración y validación de los protocolos el órgano encargado será la comisión permanente de farmacia del consejo interterritorial del sistema nacional de salud en la que estarán representados tanto el ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad como las comunidades autónomas los órganos

las mutualidades y funcionarios y el ministerio de defensa y las funciones serán las siguientes establecer los criterios generales y la estructura y contenido mínimo de todos los protocolos establecer los criterios para su evaluación

y promover los protocolos considerados de especial interés para el sistema nacional de salud

y con participación multidisciplinar de médicos y enfermeros y en lo que respecta a la acreditación a los requisitos para la acreditación de los profesionales que serán otorgadas por la dirección general de ordenación profesional del ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad son los siguientes

en el caso de cuidados especializados se requerirá también el título de enfermería especialista

mediante el correspondiente programa formativo para cuidados generales

el procedimiento que se iniciará obviamente a solicitud del interesado tendrá un plazo máximo de seis meses y la acreditación tendrá efectos en todo el estado

de uso humano en el momento de la entrada en vigor de este decreto dispondrá de un plazo máximo de cinco años para

contempladas en la normativa también se establece que con carácter excepcional los enfermeros que hasta la entrada en vigor del real decreto

podrían acceder a la acreditación cursando una solicitud con el correspondiente certificado del servicio de salud en el que el interesado haya adquirido las competencias

que se indican por lo tanto este decreto ha sido promulgado dictado en función de las competencias exclusivas que tiene el estado en virtud del artículo ciento cuarenta y nueve punto uno punto dieciséis

de que el estado tiene competencia exclusiva sobre la siguiente materia bases y coordinación general de la sanidad legislación sobre productos farmacéuticos

de este real decreto hablando del título competencial señala claramente que este real decreto se dicta al amparo de lo previsto

que atribuye al estado competencias exclusivas en materia de bases y coordinación general de la sanidad

se ha promulgado este real decreto para esta regulación concreta por lo tanto señorías estamos hablando de una competencia exclusiva obviamente cada administración y cada gobierno como lo han hecho gobiernos autonómicos y como han

el gobierno vasco ha solicitado la suspensión cautelar concretamente del precepto del artículo tres punto dos que además esa suspensión ha sido

la situación en cuanto a la capacidad competencial de poder promulgar un decreto de estas características por lo tanto a la legislación y a la legalidad prevista se ha intentado con ello mejorar la seguridad legal y la seguridad del personal de enfermería

porque sin duda contribuye a mejorar la seguridad jurídica de los profesionales y pacientes

se han regulado aspectos que no estaban regulados con anterioridad la regulación de la indicación uso y autorización dispensación de medicamentos

histórica y también se regula como he hecho referencia al repasar el contenido del real decreto la elaboración de protocolos guías de práctica clínica para la acreditación de profesionales estos profesionales el profesiones de enfermería gozará ahora de previa acreditación de la competencia de uso

de productos sanitarios que ahora no estaba reconocido que hasta ahora de la regulación del citado real decreto no estaba prevista y la competencia de indicación y uso en medicamentos sujetos a prescripción médica se establece teniendo en cuenta la seguridad del proceso y del paciente y está protocolarizada y requiere de las instrucciones de tratamiento que deben figurar en la historia clínica según la ley cuarenta y uno barra dos mil dos de autonomía de pacientes por lo tanto queda

el ámbito de actuación de cada uno de los profesionales que interactúan en la sanidad pública sí quería hacer referencia a otras cuestiones que también

por parte interesada y sobre todo de algunas

portavoces sanitarios que es el tema de la vacunación porque cuando paciente precisa ser vacunado por la

epidemiológico es decir un viaje por ejemplo a un país extranjero en el que se puede identificar un riesgo es un profesional con competencia en virtud del artículo setenta y nueve punto uno del real decreto uno barra dos mil quince

normalmente obviamente un médico el que prescribe una vacuna

ya que se trata de un medicamento sujeto a prescripción y precisa por lo tanto al estar sujeto a prescripción de esta prescripción y otra cosa bien distinta es una campaña de vacunación como puede ser la gripe en la que ante un riesgo epidemiológico se da instrucción por parte de la autoridad sanitaria en consecuencia y cuando se vacuna a la población en el marco de una campaña de vacunación como puede ser la gripe

la autoridad médica fruto de la decisión de la autoridad sanitaria por un

detectado y en aras a preservar la salud médica no se requiere un diagnóstico previo puesto que

riesgo claramente identificados por lo tanto señorías con el citado real decreto el colectivo d enfermería

no sujetos a prescripción médica y de productos sanitarios que hasta ahora no estaba regulado ni reconocido por lo tanto se da de mayor seguridad jurídica al colectivo de enfermería frente a lo que se ha tratado

queda absolutamente delimitado el ámbito de actuación de ambos profesionales y se ha intentado claramente subsanar una laguna legal existente mejorar la seguridad jurídica de todos los profesionales y los pacientes a lo largo de todo el proceso asistencial regulando aspectos que no estaban regulados yo sí tengo que decir que como he dicho

en otras ocasiones está la posibilidad de plantear recurso se han planteado

en concreto y como se dijo aquí por parte de las comparecientes que hemos tenido

las propias enfermeras el colectivo de enfermería los médicos solo se ha pedido la suspensión del

supremo por lo tanto quiero decir que la iniciativa de cada comunidad autónoma de cada entidad de cada organización

unos intereses determinados o la defensa de unos derechos se ha podido ejercer y por lo tanto

para resolver y dictaminar y en ese sentido las suspensiones cautelares que se han solicitado han sido denegadas pero creo que hoy dos grupos yendo de la mano otra vez como son eh bildu y el partido

presentan una iniciativa absolutamente demagógica

exclusiva y sobre todo me llama mucho la atención que el partido socialista haya presentado esta iniciativa porque si el partido socialista un partido

de ámbito estatal no está de acuerdo con una regulación concreta como ha podido estar de acuerdo con otra regulaciones que por cierto también

a la regulación concreta del copago que se hizo también obviamente

suspensión pero si el partido socialista que obviamente es un partido que tiene posibilidades de gobierno aunque sean lejanas

de españa y posibilidades frustradas como vimos en sus intentos

hace pocos meses lo que tiene que hacer es si llega al gobierno cambiar las cosas pero me parece absolutamente demagógico

que se sabe que no se tiene título competencial porque eh bildu ya sabemos dónde está pero que el partido socialista presente una iniciativa cuando se sabe que no se tiene título competencial y que estamos hablando de una competencia exclusiva del estado pues también nos da

de cómo están las cosas en el partido socialista en el partido socialista de euskadi en el partido socialista en su conjunto es una iniciativa señorías que no tiene recorrido y ustedes lo saben no tiene recorrido y desde luego nosotros la encuadramos claramente en una actitud y en una posición de postureo electoral y además creo que es engañar a los ciudadanos y creo que es engañar

porque es frustrar unas expectativas que ustedes saben claramente antes de presentar esta iniciativa que por cierto se podían haber molestado en cambiar alguna terminología porque creo que ha sido calcada de otra iniciativa también presentada por el partido socialista

a la terminología propia de nuestra comunidad autónoma por lo tanto señorías por todas las razones que acabo de esgrimir y argumentar votaremos en contra de la proposición de ley presentada por el partido socialista y eh bildu

para responder brevemente a la representante del partido popular que

de una defensa de un debate que no era el que estaba hoy presentado aquí

veníamos a hablar de otra cosa veníamos a hablar de una proposición de ley a la que no se ha referido prácticamente y para hacer una crítica a las posibilidades frustradas del gobierno o del perdón del partido socialista de gobernar frente a la imposibilidad del partido popular de poder gobernar

esa es un poco la alternativa no a mí me ha sonado desde luego su intervención a pataleta y a lugares fuera de toda duda y de todo común no tratábamos de eso en fin creo que el decreto novecientos cincuenta y cuatro barra dos mil quince

usted dice que viene a dar al comportamiento de enfermeras y enfermeros el día la conmemoración

de la enfermería del país vasco las tres presidentas de los colegios médicos de enfermería han solicitado la derogación de este mal decreto

donde antes no existían claro usted ve

cuando todos los demás colectivos los implicados y los responsables solo vemos conflicto solo vemos problema para los profesionales para trabajar en equipo y desde luego lo que nos preocupa al final mayores problemas para los pacientes puesto que se derivan se derivan por la falta de la posibilidad de colaboración de equipo entre médicos y enfermeras

en mayores listas de espera para atender a los pacientes dígame usted dónde se encuentra el decreto a juicio de todos los demás solo ustedes son los ciegos que no ven la realidad

engainatzea señora ubera le decía claramente que desde luego lo que hacemos desde el partido popular el partido popular en madrid también es mirar por los intereses de los

en euskadi y desde luego creo que ustedes flaco favor hacen a la ciudadanía vasca cuando presentan iniciativas que saben que no tienen ningún recorrido

que generan falsas expectativas y que además son absolutamente demagógicas y lo mismo para el partido socialista señora roncal es que además

el sindicato médico de euskadi cuando tuvo el honor de comparecer en este parlamento que parecía mentira que una persona

y con todo el respeto que le tengo y que merece obviamente que plantee las cuestiones

que usted debería de conocer las lagunas y las deficiencias que existían en la regulación hasta ese momento desde luego

en muchos ámbitos no sabe hacer las cosas bien pero desde luego en materia sanitaria ha sido un caos ahí está la deuda

de deuda en el sistema nacional de salud

la petición de suspensión y la regulación que se quiso hacer por parte del copago y del gobierno de patxi lópez fue denegada

y usted lo sabe establecía criterios más justos porque no se estableció por primera vez un copago el copago ya existía el copago farmacéutico

y sabe usted que con los gobiernos del partido socialistas los parados de larga duración pagaban el cuarenta por ciento de las medicinas pues fue el gobierno del partido popular el que hizo que precisamente el sistema fuese mucho más justo y equitativo y equilibrado

que se ponderara el criterio de renta y como le digo con ustedes los parados de larga duración pagaban el cuarenta por ciento de las medicinas y con el partido popular no por lo tanto ahí están los hechos quizá ahí están los hechos que al final los ciudadanos lo tienen tan claro que al final

capacidad de pronunciarse ponen a cada uno en su sitio y como decía la actitud de eh bildu pues ya la conocemos la desobediencia

llamativo por no calificarlo de otra forma y evidencia a que el partido socialista no solo a nivel estatal sino a nivel de euskadi está claramente desorientado es que plantea una regulación en una competencia que es estatal hagan ustedes como han hecho en la junta de andalucía pedir la suspensión por cierto no de todo el real decreto de solo el punto tres punto dos del real decreto hagan ustedes eso donde gobiernan hagan ustedes eso

eso sí el tribunal supremo les ha denegado la suspensión o intenten cambiar las cosas si ustedes tienen posibilidades de estar en un gobierno pero desde luego me parece

demostrativo del partido socialista que tenemos y el rumbo que está tomando el partido socialista que vaya de la mano de eh bildu en una iniciativa planteando

una actitud de desobediencia y de extrapolación de las competencias que tenemos cuando usted sabe que claramente estamos hablando de una competencia estatal y hasta día de hoy entiendo que el partido socialista de euskadi se engloba dentro del partido socialista que es un partido estatal besterik gabe

presidenta explico brevemente por qué finalmente nos hemos abstenido nos hemos abstenido porque por un lado compartimos las reivindicaciones planteadas

esta iniciativa compartimos sus reivindicaciones compartimos digamos sus principios políticos en lo que tiene que ver con la defensa de los profesionales sanitarios y de los enfermeros y de las enfermeras y por otro lado porque estamos en contra del decreto aprobado por el ministerio de sanidad que

más o menos reciente limita el papel de los enfermeros y de las enfermeras a la hora de prescribir medicamentos y utilizar otros productos sanitarios en el desarrollo

estamos en contra de la aplicación de parches locales o autonómicos para corregir los errores o las decisiones equivocadas tomadas por parte del gobierno de españa pensamos que este no es el camino apropiado porque esto lo que en última instancia provoca es que se incremente la desigualdad entre los ciudadanos españoles y creo que este es un mal camino que

en los últimos tiempos esta idea ha sido abrazada por otros partidos políticos que en su momento fueron partidos políticos nacionales y hoy ya han dejado de serlo y evidentemente me refiero en este caso al partido socialista no puede ser que se traslade la idea de que españa no es un país sino diecisiete yo creo que si efectivamente el gobierno de españa está tomando decisiones en el ámbito de sus competencias que son claramente equivocadas

o que no compartimos lo que hay que hacer y al menos hay que hacerlo así en este caso es ir al congreso de los diputados derogar el decreto que no

nacional de prescripción de enfermería creo que esto es lo que debería hacerse como digo en lugar de implementar parches autonómicos que no hacen sino fomentar la desigualdad entre conciudadanos españoles por eso finalmente nos hemos abstenido porque criticamos

pero estamos en contra del incremento de la desigualdad en españa y de que los partidos políticos supuestamente nacionales en concreto hoy el partido socialista se comportan finalmente como si fueran partidos políticos

enfermera lo que tienen que hacer ustedes es trasladarla al congreso de los diputados cuando se constituya y derogar a partir del día veintisiete de junio este decreto que mayoritariamente la sociedad española entiendo yo que no comparte de hecho durante estos cuatro o cinco meses de campaña electoral subvencionada con dinero público que ustedes han utilizado en su propio beneficio incluso tuvieron la ocasión de aprobar una iniciativa para proponer

y proponer algunas de las ideas que ustedes han plasmado en esa proposición de ley

es de derogar ese decreto aprobar esa ley nacional a partir del veintisiete de junio en fin estas son por lo tanto las razones por las cuales

pensamos que hay que aprobar una ley nacional de prescripción de enfermería y pensamos que hay que derogar este decreto pero esto hay que hacerlo en el congreso
de los diputados nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna

a la conveniencia o no de la tramitación urgente creemos que las prisas son malas compañeras

o el copiar y pegar textos de otras comunidades y traerlas a nuestro parlamento

ni la situación son las mismas y entendemos que ejercitar nuestras competencias autonómicas no significa que tengamos traer o copiar textos legales de otras comunidades para aplicarlos en la nuestra

sí gracias presidenta los campus de bizkaia y álava

convocada por el sindicato ikasle abertzaleak

a un vigilante y varios destrozos en vitoria los participantes en la protesta entraron en la sede del vicerrectorado y causaron también daños materiales

disciplinarios abiertos y las imputaciones a varios alumnos por los graves

en vitoria y bilbao durante la celebración de una huelga

batalla campal la upv condenó estas prácticas violentas y tanto el lehendakari como el parlamento vasco representantes de los ciudadanos debemos igualmente condenarlas dado que no es admisible que estas prácticas se reproduzcan del tiempo y de ahí la interpelación que registramos en su momento y la moción que registramos y que defendemos hoy estos actos violentos son inaceptables en una democracia

por las instituciones democráticas y por todos aquellos que nos consideremos demócratas una cosa es reivindicar

que puedan tomar aquí o allá los diferentes gobiernos y otra muy diferente y algo totalmente inaceptable es llevar a cabo actos violentos para presionar

porque además estos hechos son continuación de hechos anteriores igualmente violentos porque estos hechos se están repitiendo con demasiada asiduidad durante los últimos meses por ello interpelábamos al lehendakari por el modo en que el gobierno vasco piensa hacer frente a este tipo de actos violentos

cada cierto tiempo y que como digo son absolutamente inadmisibles la interpelación que registramos en su momento tristemente se vio reforzada por otro ataque provocado tras su presentación tras lo ocurrido en la madrugada del dos de mayo cuando

las instalaciones del vicerrectorado del campus de álava la realidad es que los violentos han desplegado durante los últimos meses toda una estrategia contra

para sabotajes bengalas y botellas con gasolina en las proximidades del campus vitoriano

encapuchados pararon un autobús lo pintaron volcaron contenedores y colocaron pancartas el diecisiete de marzo

grupos de radicales provocaron graves destrozos en varias facultades alavesas y después se dirigieron hacia el centro de vitoria donde protagonizaron una batalla campal y daños materiales que se acercaron

la upv reaccionó denunciando estos hechos y abrió varios expedientes a estudiantes involucrados en estos incidentes la organización ikasle abertzaleak convocó para el veintiséis de abril una jornada de lucha bajo el lema erasorik ez

y del campus de álava el resultado el mismo de las jornadas anteriores graves incidentes y destrozos en el vicerrectorado de álava y en el campus de leioa donde además agreden a los vigilantes jurados y provocan diversas contusiones y heridas a siete de ellos y el último incidente el incendio con neumáticos en la puerta del vicerrectorado del campus

el denominador común de todos estos ataques e incidentes es la organización ikasle abertzaleak y quienes siguen utilizando la violencia para tratar de imponer sus ideas quienes siguen sin

la violencia o el terrorismo para tratar de imponer sus ideas este supuesto sindicato estudiantil en concreto aparece siempre en las jornadas de protesta en las algaradas y en los ataques violentos lo dejan claro sus propios lemas y eslóganes como queda demostrado

destruir construyendo y construir destruyendo muy significativo

de lo que busca y de lo que es esta organización estos han sido los hechos un relato que nos retrotrae a fechas pasadas cuando la violencia era una constante no solo en la universidad y una herramienta perfectamente diseñada

amedrentar a todos aquellos que no pensábamos como ellos un mecanismo de refuerzo de la estrategia de limpieza ideológica llevada a cabo medio siglo por la banda terrorista eta no es admisible

del tiempo cualquier acto de violencia es inadmisible e injustificable en democracia no es un asunto menor por mucho que en el pasado más o menos reciente hayamos vivido un terrorismo que haya provocado víctimas mortales centenares de víctimas mortales que finalmente vengan ocurriendo estos hechos que pueden definirse como kale borroka nos un tema menor y por lo tanto lo que proponemos es que este parlamento salga al paso y diga claramente que estos comportamientos son absolutamente injustificables por ello todos los demócratas de forma individual y colectivamente

apoyar el aislamiento social de quienes protagonizan estos hechos y propiciar su persecución por las fuerzas policiales es básicamente lo que queremos

las fuerzas democráticas de este parlamento consensuamos una declaración de condena en la que señalábamos que asaltar centros universitarios amedrentar a docentes y alumnos destrozar

actuaciones incompatibles con el derecho democrático a la manifestación y la protesta este pronunciamiento no se pudo convertir en declaración

se negaron a firmarla pero también hay que hacer una crítica a la propia universidad

contundente con estos individuos que periódicamente siembran el caos y violentan el normal desarrollo académico

y son muchos los docentes que lo han denunciado y que lo siguen denunciando se dice además que hay un acuerdo entre la upv

en los campus universitarios a no ser que lo requiera el rectorado

no haya sido requerida la actuación de la policía vasca esto también nos parece grave preguntamos sobre la cuestión a la consejera pero lo cierto es que en relación a este asunto concreto no contestó nada por ello en su momento como digo interpelamos al gobierno para saber también el gobierno y el departamento de seguridad qué piensa hacer a partir de ahora que no haya hecho hasta ahora que estos hechos vuelvan a suceder más allá de que evidentemente aquí los responsables son los que actúan de ese modo evidentemente tenemos un gobierno democrático unas competencias claras al que hay que exigirle lógicamente resultados concretos y lo cierto es que estos incidentes estos altercados estas actuaciones violentas se han venido repitiendo en el tiempo por eso planteamos y seguimos planteando

que el gobierno y que el departamento de seguridad y que la ertzaintza mejore sus actuaciones en el futuro

no puedan volver a suceder finalmente y era un propósito que yo tenía desde el inicio todos los grupos

democráticos hemos conseguido firmar una transaccional una transaccional que pretende que este parlamento exprese

a los ataques y actos violentos perpetrados en los campos de leioa y vitoria

en el seno de la upv una transaccional para que este parlamento

a la upv una transaccional para que este parlamento reitere su llamamiento a instituciones y sociedad en general a ratificar un compromiso inequívoco en contra de la violencia y a trabajar para que hechos como los ocurridos

no se vuelvan a producir y finalmente una transaccional para que este parlamento

puedan volver a ocurrir en el futuro en fin hemos tratado de alcanzar el mayor consenso posible

que lo fundamental de lo que podemos defender los demócratas estuviera recogido finalmente en la transaccional y que independientemente de quién finalmente firmara la transaccional fuera un acuerdo que lograra mayor apoyo posible por parte de este parlamento esto es lo que yo he tratado de hacer

de partidos políticos una transaccional democrática contundente clara que denuncie los hechos que condene las actuaciones violentas que inste al gobierno a mejorar sus actuaciones y a la propia

pero ya digo que pueda ser una transaccional que logre el mayor apoyo posible por parte de este parlamento vasco incluso la unanimidad

gracias presidenta voy a centrarme en el objeto de debate a pesar de que hay veces que

absolutamente alucinante en fin voy a decirle señoría que quiero creer que en esta cámara existe

unanimidad en la idea de que este país necesita una

con memoria y precisamente por eso porque tenemos una memoria muy amarga de lo que ha sucedido y de lo que ha sido nuestro pasado reciente es por lo que tenemos que poner todos los medios para que no vuelva a repetirse y esa es la razón por la que el grupo socialista ha firmado la transacción aunque he de decir que me gustaba muchísimo más

y la ha firmado para condenar los actos de violencia

en nuestros campus universitarios la ha firmado para promover una vez más en la sociedad vasca un compromiso colectivo en contra de estas actitudes

y también para expresar un respaldo inequívoco

a pesar de que le instemos a mejorar su actuación para hacer a este tipo de actuaciones en defensa como digo de la legalidad democrática y de la ciudadanía yo creo señorías que debemos ser muy muy claros y muy tajantes cuando ocurren hechos de violencia de coacción

estos últimos meses en los campus de leioa vitoria y en las calles de la capital alavesa conocemos todos muy bien sabemos lo que ha sido el terrorismo y muy especialmente sabemos lo que ha sido el terrorismo callejero conocemos perfectamente cuáles han sido sus efectos que no son otros que la intimidación constante a los ciudadanos en la vía pública las agresiones a la libertad de expresión

en definitiva de los derechos de todos en beneficio exclusivo de los más brutos y animales del lugar sabemos todo eso

no queremos que ese pasado siniestro vuelva a este país la democracia no ha derrotado a eta para que vuelvan quienes tratan de imitarla intentando reproducir sus métodos de imposición totalitaria no queremos que con eta fuera de juego el terrorismo callejero se nos cuele por la

no queremos que las minorías violentas vuelvan a acostumbrarnos a sus coacciones y a su sinrazón no queremos volver

o cuando determinadas zonas de nuestros pueblos y ciudades

nacionales vedadas para quienes no comulgaban con la causa y no queremos que la universidad del país vasco se convierta en una nueva

en la que solo unos hablan y gritan mientras los demás callan probablemente por miedo no queremos que nuestra universidad vasca se convierta en una especie de aldea gala que les pueda quedar a los nostálgicos y añorantes de los viejos tiempos

de la kale borroka y menos

que se mueven alentados por la organización ikasle abertzaleak de quienes proclaman que destruir construyendo es construir

perfecto intentamos quemar el vicerrectorado provocamos

y agredimos a los trabajadores de la universidad esta actitud señorías es una actitud imbécil porque recuerda muchísimo a la anécdota de aquel recluta

y cuando le preguntaban por qué hacía eso respondía impasible para que se joda el sargento

pues aquí es más o menos lo mismo para protestar con una ley que deteriora la calidad de la enseñanza la deteriora un poco más

puede protestar por esa carencia de recursos que yo mismo he contribuido a aumentar

es la ideología de la destrucción que eta ha venido alimentando en nuestra sociedad es una ideología reaccionaria porque es reaccionario no tiene otra palabra atentar contra bienes públicos que pagamos los contribuyentes

y también y seguro que en mayor medida quienes no lo hacen porque no pueden aquí no estamos hablando ni siquiera de una revolución estamos hablando de una

de unos niños que están buscando una identidad que es que solo parecen encontrarla cuando

de violencia y en la imposición totalitaria esa señorías es la identidad que proporciona la manada es la identidad y la brutalidad

y esa identidad uniforme y uniformada que eta ya nos quiso imponer la conocemos perfectamente nos gusta no nos gusta nos quedamos con la identidad de la ciudadanía democrática que no es otra cosa que el pluralismo el respeto entre diferentes

otorgado todos parece poco pero no es ni nada más ni nada menos y esa es la razón
por la que hemos firmado esta enmienda transaccional para la que solicitamos el apoyo de esta cámara gracias eskerrik asko gallastegui andrea

por lo tanto esta enmienda no va en contra de la autonomía universitaria no puede entenderse

autonomía universitaria cuando desde su primer párrafo muestra su apoyo a toda la comunidad universitaria y desde luego muestra su apoyo por supuesto a la autonomía universitaria no estamos hablando de eso estamos hablando de la defensa de un principio básico en democracia y que debíamos de tener claro y que a veces corremos el riesgo de parecer que estamos banalizándolo pero es que hay cosas que son

clara es que no se puede admitir ni defender la utilización de la violencia la utilización de la amenaza la utilización del acoso para defender una idea del tipo que sea o para plantear una crítica

por mucho que nos parezca injusta y eso es lo que viene a hacer esta enmienda de transacción manifestar

articulan una sociedad sana y una sociedad democrática creo que la enmienda de transacción que hemos firmado sería perfectamente asumible de los grupos de esta cámara es más diría que lo que

enmienda de transacción dice no solo debiera ser asumible sino que ha sido asumida públicamente por todos los grupos

hoy en día somos una sociedad más sana con una mejor convivencia de lo que era hace

por eso además de condenar una vez más estos hechos además de denunciar el uso de la violencia

una idea sea política sea económica sea social o hacer una crítica a las leyes quisiera poner en valor el trabajo

en favor de la convivencia que va desde como

la participación en numerosos proyectos que favorecen la convivencia en este país hasta como decía el señor maneiro también la apertura de expedientes a los

alumnos que protagonizaron los primeros incidentes que además expedientes que dieron lugar a continuar por eso vía que se pretende evitar y también poner en valor

y en la persecución de estos delitos esto es poner el foco donde corresponde y el foco en este caso es ponerlo en la existencia de personas en este país todavía que creen que se puede defender idea a través de la violencia

de todos los partidos políticos de todas las instituciones

académicas culturales terminar con esa cultura arrumbar de una vez por todas esa cultura de la violencia esa cultura de la imposición en la defensa

esta es la aportación que desde el grupo nacionalista vasco pretendemos hacer con la firma de esta enmienda y con todos los trabajos que venimos desarrollando como sociedad y como instituciones en favor de la convivencia en esta país porque si tan alto y tan claro

que no se puede permitir y que tenemos que luchar en estepaís contra la existencia de una cultura que ha estado arraigada mucho tiempo de admitir y defender

tenemos hoy como decía antes una sociedad más sana y una sociedad que trabaja más hacia la convivencia que tiene más claro esos principios y desde luego ahí vamos a estar y debemos de estar

en la defensa de estos proyectos nada más y muchas gracias eskerrik asko

señora presidenta señor isasi le voy a contestar

verdad pues que no me corte a mí tampoco mire

solidaridad ninguna solidaridad ninguna solidaridad con quien ha reconocido pertenecer a la banda terrorista eta

él mismo a una banda terrorista que se encargó de asesinar de torturar de secuestrar de extorsionar de amenazar a la sociedad vasca y al resto de la sociedad española con ellos

con quien ha reconocido pertenecer a una banda terrorista que ha hecho todo eso

ninguna señor isasi ninguna y con respecto a su intervención le voy a decir una frase que suelen decir mis hijos qué fuerte qué fuerte qué rodeos para

una vez más negarse a lo que todos los demócratas vemos tan claro y teñirlo de obsesión partidista no perdone señor isasi obsesión democrática

de verdad usted cree que es una obsesión partidista condenar los actos violentos entendemos la democracia de formas muy diferentes intervenciones como la suya hoy aquí ponen de manifiesto que a ustedes les queda

mucho todavía para entender lo que es la democracia porque lo que está viviendo la universidad es una sucesión de actos violentos y no solo en la universidad

y hay muchos antes y muchos esperemos que no vengan después

material en las inmediaciones de la universidad a mediados de marzo

jornada de huelga que se salda con destrozos en el campo de la upv y en el centro de vitoria

condena la violencia empleada y la intimidación que se utiliza contra el personal docente y sus propios compañeros de estudio que no habían querido acogerse al derecho a la huelga porque ustedes los derechos algunos los entienden como obligaciones

los piquetes encerraron a varios estudiantes que habían acudido a clase y amenazaron

y que no pudieron desarrollar su labor profesional ante la actitud agresiva de los mismos

pero como le decía esos altercados traspasan la universidad

arrojando piedras pilas bengalas tornillos canicas de gran tamaño estos destrozos

histórico el saldo fue nueve detenidos un herido y cuantiosos daños a entidades bancarias mobiliario urbano y también en el interior del recinto universitario tras estos hechos

responsabilidades producidas en el campus de vitoria y por las actitudes agresivas y amenazadores vertidas en el personal universitario pero ha habido más hechos violentos como ha dicho el señor maneiro

de la upv ubicado en leioa después de que un centenar de jóvenes secundara una manifestación convocada por ikasle abertzaleak bajo el lema como él ha dicho erasorik ez no más ataques y la madrugada del dos de mayo por tercera vez se ataca el vicerectorado

como vemos aunque lo último es verdad que no está no ha sido reivindicado pero los anteriores todos los anteriores tienen un denominador común el sindicato

un sindicato cuyo objetivo en estas manifestaciones iba mucho más allá

construir destruyendo y hay que decir que no que su objetivo es destruir porque destruyendo no se construye absolutamente nada no se consigue más que eso

y esto nos recuerda como también se ha dicho aquí a otras épocas

por mucho que algunos como se mantuvieron cómplices como incluso jalearon en ese pasado

que nunca ha existido pero estuvo ahí estuvo ahí y nos recuerda a actos violentos que había en la universidad y en las calles de euskadi de ataques a la ertzaintza y a otros cuerpos de seguridad de ataques a bienes de ataques

de ataques a personas por el simple hecho de pensar diferente nos recuerda

la utilización de la violencia para conseguir objetivos políticos

le suena lo de construir no pero que solo conseguía destruir destruir vidas destruir familias destruir proyectos una violencia constante en las calles y utilizada como una herramienta para amedrentar

y todo ello como le digo secundado y jaleado siempre por los mismos y por supuesto jamás condenado ni siquiera a día de hoy

y una vez más esa falta de condena vuelve a existir

para una vez más no condenar de verdad que parapetarse detrás de la autonomía universitaria para no condenar

fuerte como se ha dicho en esta cámara no se pudo llevar a cabo una declaración institucional de condena

se opusieron señalaron que es que se criminalizaba el movimiento estudiantil y que no se podía empañar la justicia de las reivindicaciones

y exigieron que se esclareciesen las denuncias de las acciones violencias de extralimitación policial denuncias

se presupone de forma absolutamente e infundada e injusta

policial y mire la violencia no es admisible en democracia la violencia es injustificable e intolerable siempre y el recurso a la violencia debe de ser condenado siempre la protesta la manifestación en no estar de acuerdo la reivindicaciones claro que son un derecho un derecho un derecho que se puede ejercer y que se debe ejercer

que están en desacuerdo con las decisiones que se toman pero es incompatible esa protesta es incompatible ese derecho de manifestación con el destrozo de bienes públicos con altercados en las calles y con amenazas a profesores a alumnos y al resto de la ciudadanía todo aquel que se considera demócrata condenar la utilización de la violencia todas las instituciones deben alzar la voz ante la utilización de prácticas de destrucción de coacción y de amenaza como eran estas no ejercicios de autonomía universitaria señor isasi todos los representantes públicos debemos apelar pacífica a la tolerancia y a condenar los actos que quieran acabar con ello por eso nosotros estábamos no presentamos enmienda porque estábamos totalmente de acuerdo con la

y estábamos de acuerdo con ese primer grupo que lo que viene a recoger es esa necesidad de condena sin ambages sin medias tintas sin peros sin rodeos sin autonomías universitarias como escusa señor isasi los ataques y los actos violentos acaecidos en los campus universitarios de leioa y de vitoria

a propósito aquí de un partido de futbol la consejera apelaba a la importancia de la prevención pues bien también en este aspecto hay que apelar a la prevención y hay que apelar en un doble sentido

que esos comportamiento se den que esos comportamientos violentos

concienciar perdón que ninguna causa ninguna protesta ninguna reivindicación

hay que inocular a los jóvenes frente a la tentación de volver a otras épocas

consideramos necesario concienciar a los estudiantes de la universidad

un espacio de tolerancia de entendimiento de respeto de convivencia que es el centro de la formación e investigación y que como tal hechos como estos no se pueden volver a producir

todos partidos políticos sindicatos debemos trabajar para conseguir que la universidad sea de verdad eso un espacio de convivencia y democracia y que no se repitan hechos como y por otra parte se debe velar por la seguridad de los estudiantes y de docentes de dotar de seguridad a la ciudadanía y ahí el responsable

se ha dicho aquí que es verdad que hasta que no se autoriza

desgracias en caso de que hubiera que exigir responsabilidades porque hubiera fallado la seguridad a quién se les haría esas reclamaciones la ciudadanía quién demandaría que interviniese

para asegurar para dar perdón seguridad a los docentes para dar seguridad al personal

a quién se le hubiera pedido que hubiese dado esa seguridad de verdad se creen que la ciudadanía hubiera entendido que por una falta de permiso no hubiera podido

yo creo que eso debemos de planteárnoslo por eso yo también estaba de acuerdo con el tercer punto en cualquier caso creo la enmienda de transacción presentada recoge todo eso estamos absolutamente de acuerdo y es más tal y como se ha dicho aquí creo que nadie que se llame demócrata y que crea que la violencia no tiene ninguna justificación ni la ha tenido nunca desde luego

sí gracias presidenta señor isasi me va a desgastar el apellido

otra cosa tantas veces como sea necesario pero al menos una diga que condena las actuaciones violentas los hechos que vamos a condenar todos los demócratas

determinadas actuaciones violentas ocurridas en la upv esto es lo que se le pide y usted ha utilizado todo tipo de excusas todo tipo de rodeos no apoyar esta transaccional que es una transaccional firmada por diferentes partidos políticos nacionalistas no nacionalistas autonomistas de derechas o de izquierdas evidentemente a mí también me gustaba más

original pero lo que pretendía hacer es llegar a un acuerdo lo más amplio posible que tratara de buscar incluso la propia unanimidad de la cámara y de esto creo que es consciente el propio señor iturrate porque ayer se lo transmití efectivamente

porque eh bildu se niega a condenar actuaciones violentas este es el resumen usted dice que esto es una obsesión pero cómo va a ser una obsesión la obsesión será de quienes insisten

esto es absolutamente inaceptable vamos a defender la democracia

para que no puedan volver a ocurrir esto es lo que se pretendía no es ninguna obsesión es una cosa lógica y es una cosa muy saludable hacer este tipo de ejercicios en defensa de la democracia

es muy saludable nos viene muy bien a todos nosotros

a nosotros mismos y después al conjunto de la sociedad es mejor condenar el terrorismo que no condenarlo señor isasi condenar el terrorismo es algo muy muy saludable yo se lo aconsejo no hable de autonomía universitaria que aquí en ningún momento se ataca dicha autonomía rodeos no hable de obsesiones han ocurrido una serie de actuaciones violentas y aquí está en fin la representación de la sociedad

que va a votar a favor de esta transaccional amplia que hemos conseguido pactar con todos los partidos políticos menos con ustedes porque ustedes no quieren decir yo condeno estas actuaciones no quieren dar este paso señor isasi no me insulte no me ponga como ejemplo

a una banda terrorista no ponga ese ejemplo está insultándome a mí y al conjunto de la sociedad cómo va a ser un ejemplo un

no entiende que esto es un insulto a la democracia a la sociedad decente cómo puede poner ese ejemplo mi ejemplo señor isasi son las víctimas del terrorismo los concejales del partido popular y el partido socialista de euskadi que hicieron frente al terrorismo de eta y que decidieron

plantar cara y no permanecer callados mi ejemplo son los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que han defendido defienden y seguirán defendiendo la democracia eso son mis ejemplos la sociedad decente los ciudadanos que decidieron

hoy decir que no a cualquier tipo de actuación violenta o terrorista ese es mi ejemplo mi ejemplo no puede ser un miembro de eta señor isasi

poner como ejemplo o tratar de poner como ejemplo de cara a la sociedad a un exmiembro

es un insulto a la sociedad democrática sobre todo si a continuación ustedes no dan el paso de condenar estas actuaciones violentas y que conste que

transaccional o una transaccional semejante a esta pudiera aprobarse por unanimidad pero efectivamente ha sido imposible como decía el señor

pero ciertamente hay determinadas cosas que tienen que decirse de nuevo

de acuerdo no ha sido posible pero están ustedes todos de acuerdo con las palabras trasladadas por el señor isasi son todos un bloque ninguno de ustedes va a condenar el terrorismo señor matute señora blanco

a favor de esta transaccional van a votar a favor de esta transaccional o se van a plegar a las tesis rancias y de siempre de toda la vida de batasuna

en este caso un servidor haga determinadas declaraciones o diga cosas en relación a eh bildu ustedes no alcen la mirada como diciendo no

votar de manera separada o háganlo directamente es una transaccional perfectamente democrática razonable que lo único que pretende es condenar unas actuaciones violentas decir que esto es inadmisible y que vamos a defender todos juntos

ya digo firmada por todos los grupos democráticos de la cámara izquierda nacionalistas no nacionalistas personas de todas las ideologías a las que evidentemente agradezco su participación en la elaboración de esta iniciativa

no siempre que se haga referencia a una persona da turno de alusiones hay que

no no hay que leer el reglamento porque no siempre que se haga referencia hay turno de alusiones una cosa es que se haga una pregunta en alto a una persona pero eso no da turno de alusiones

es que usted persiste en el error señor isasi es decir sigue dándole vueltas a la misma mandanga

lo primero que le quiero decir es que siguen ustedes desaprovechando todas esas oportunidades que tienen que se les dan constantemente

y que reconozcan una serie de hechos que son constitutivos de violencia pura y dura esto de rechazamos o el parlamento ya rechazó su enmienda de totalidad

era exactamente un bluf usted no le cuesta nada en estos momentos firmar o si no firmar apoyar

porque reconocer lo que pone en esa enmienda sería reconocer que ustedes tienen un pasado que no es el correcto siguen ustedes teniendo esas cosas por detrás es que hay veces que no solamente se me paran los pulsos si no es que

no viene a cuento para nada cuando en definitiva él ha sido quién utilizando la legalidad democrática

que da el estado de derecho a las personas inculpadas ha tenido una reducción de la pena absolutamente importante que le permite entrar en la trena que es

también va aparejada a eso como sabe aquí todo el mundo que tenga un poquito de sentido común o sea que por favor lo único que puedo solicitarle es que deje de

menear de mezclar las churras con merinas y simplemente

y eso significa reconocer que ikasle abertzaleak o miembros de ikasle abertzaleak campan por sus suelos en la calle

como animales de bellota eso es lo que hay y que ese tipo de conductas tienen que rechazarse condenarse y no se pueden permitir porque durante muchos años

y mientras no haya unanimidad o una absoluta unión de todos no solamente de los demócratas de momento sino de todos que a ser demócratas en ese caso sí no vamos a conseguir

no se vuelvan a repetir nunca tenemos memoria

y de hecho la pide la memoria es para todos

abestiaren musikan dabilela un dos tres un pasito palante maría

gracias de nuevo señora presidenta

no sé si es que soy la que menos candor tiene en esta cámara yo presuponía que era el señor maneiro pero le veo como más

que iba a poder llegar a una declaración institucional para condenar unos altercados no unos hechos violentos de unos estudiantes

que aquí hace alusión continua a su cualidad de profesor de la upv y ha sido incapaz de condenar el asesinato de su compañero

es difícil si no es capaz de condenar un asesinato de un compañero suyo cómo va a condenar unos éxitos estudiantiles verdad unos éxitos de movilización que así fueron calificados y la verdad es que yo le he dicho alguna vez

porque ustedes una y otra vez una y otra vez aluden en dos ocasiones ha aludido usted

nunca y dice usted que le parece

me da exactamente igual y que no tengo su respeto ni esa bancada tiene su respeto también le diré que me da exactamente igual

pero no sé si tendrá también respeto tanto que habla de la upv

rector de la upv el señor manu montero que hoy hace un artículo excelente

y que yo recomendaría leer porque creo que recoge perfectamente esa estrategia de la izquierda

esa estrategia de quien que es muy diferente como él bien dice

a decir que la violencia ya no es políticamente rentable y que por eso debe abandonarse son dos cosas muy diferentes

quien se dedicó a jalear a apoyar a una banda terrorista y quien todavía siguen sin condenarla que son todos ustedes

los enemigos de la paz no somos los demás los que queremos que los terroristas

cumplan sus condenas que los terroristas confesos no estén representando a los vascos

pero en esa estrategia de la izquierda abertzale ustedes intentan hacer

y distorsionar la realidad la presente y la pasada y son capaces de decir la absoluta indignidad

y los representantes de algunos partidos políticos que hemos padecido en primera persona la amenaza terrorista no queremos que eta termine no

y ustedes no solamente no lo condenan sino que pretenden hacer creer a todos los vascos que nunca existió y existió vamos que si existió

todos los vascos así que no equivoque los términos a usted que tanto le gusta la universidad que tanto apela

el que fue rector de su universidad léase ese artículo y ahí se recoge de verdad lo que pasó no lo que cuentan ustedes eskerrik asko llanos andrea

justuki kontrakoa da espero no agotar el tiempo y así

aunque eso no les daría pie a responderme por alusiones como parece que es el caso

yo voy a intentar ajustarme al tiempo y además voy a intentar hacerlo sino se me interfiere porque se oye todo en esta cámara únicamente vuelvo a traer esta cuestión y sé que se me puede decir y ya lo digo antemano que esta es una cuestión electoral

y es verdad que vuelven a coincidir elecciones y también es cierto que volvemos a traer esta cuestión pero la traemos

que nuevamente hemos tenido que propiciar desde euskal herria bildu probablemente en escenarios futuros no seamos la única fuerza que traiga la cuestión del ttip desde el enfoque de la preocupación y de la posición contraria que actualmente trae euskal herria bildu y nos alegrará porque la foto que

se nos suele presentar luego como una foto que representa la posición

minoritaria aunque ruidosa entiendo por lo persistente de la denuncia

pero en cualquier caso yo creo que ya podemos señalar y además lo hacemos tras las dos

que parece que el desacuerdo que la desaprobación en torno al fondo incluso también

sostenida por nuestro grupo por euskal herria bildu contraria y no lo niego y sigue siendo contraria y no lo niego ni lo oculto

ciertos puntos de conexión o de encuentro o de preocupación compartida con fuerzas políticas que han manifestado en otros momentos en esta cámara una adhesión más menos inquebrantable

probablemente porque se han confirmado temores que ya conocíamos y uno era el de la opacidad

que se quiere firmar entre estados unidos y la unión europea era absolutamente opaco y era una maniobra clara para evadir la responsabilidad de lo que se estaba debatiendo y para situar el conocimiento de lo que se está debatiendo en la ciudadanía y que pudiera ya evaluar y valorar

se nos decía que no era del todo cierto que la unión europea ya establecía mecanismos para su conocimiento que a través de una página web y de un proceso de participativo europeo ya se podía acceder a toda la información se ha demostrado que no era cierto con las filtraciones de greenpeace

y eso ya no es una interpretación subjetiva o personal mía también se ha reconocido como digo por miembros de este gobierno de una o de otra manera por tanto ya hay una lectura

este proceso con todo lo opaco que ha sido con toda la falta de transparencia democrática que ha tenido que solo se ha ido corrigiendo siquiera sutilmente por la presión social

es algo más democrático algo más transparente

es que se hubiera seguido el mismo procedimiento negociador el mismo procedimiento

esa es la realidad y sin embargo ahora nos encontramos en otra tesitura

que hacíamos nuevamente uso del debate alarmista del victimismo también y de la agitación social por bandera sin justificación real que la sostuviera o la amparase bueno yo creo

no existía tanta exageración no existía tanta voluntad de crispación como voluntad de que todo el mundo de que todas las personas conocieran lo que se esconde detrás de ese acuerdo comercial y lo podemos aterrizar a lo concreto y hablábamos de los transgénicos

y hablábamos de cómo se daba cobertura las trasnacionales también a las farmacéuticas para que pudieran seguir explotando su volumen de negocio por encima de la salud de las personas o del derecho al acceso a medicamentos genéricos de las personas

si a la vez muchas de las denominaciones de origen se sostienen en pymes precisamente que ya reconocen y ya reconoce también el gobierno que pueden ser grandes damnificadas de este acuerdo si se firma tal y como se está conociendo a través de las filtraciones

del retroceso que iba a suponer en derechos sociales y laborales y decíamos que adecuar las normativas de estados unidos con la unión europea en virtud de la no aprobación de la no aceptación de determinados convenios internacionales de la oit por parte

una devaluación de los estándares de calidad en los derechos laborales y sociales de nuestra población de la población europea en el sentido más amplio y ahora vemos que también eso es cierto porque también parte dentro de las negociaciones y así podríamos seguir hablando de más pero veíamos también que la soberanía de los pueblos se podía ver seriamenteatacada

puede regular por encima de lo que puedan determinar tribunales de arbitraje compuestos por miembros

la capacidad de los pueblos dónde queda la capacidad de los parlamentos para legislar si aquello que legislen puede ser enmendado por la vía de la sanción multimillónaria a través de los tribunales especiales ahora ics antes se llamaban

y también hablábamos de la armonización regulatoria del principio de cooperación regulatoria y todo eso sigue apareciendo en el tratado

y quiero detenerme un par de minutos en el ceta porque creo que guarda relación y creo que no será motivo tampoco

de llamada al orden el ceta es un acuerdo comercial ya

pendiente de aplicación entre canadá y la unión europea ese acuerdo se terminó de negociar en el dos mil catorce concretamente a mediados

se quiere empezar a aplicar en octubre del dos mil dieciséis con motivo o coincidiendo con la cumbre canadá unión europea se ha publicado en febrero del dos mil dieciséis hasta entonces no se ha conocido nada y en ese acuerdo

ya aparece el ics ya aparece el tribunal de controversias estado inversor

para que demanden a estados soberanos si creen que las legislaciones de las que estos se dotan que se supone que dan respuesta a las demandas de la mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas agreden o

y la legislación de un estado lo impide porque genera marcos más restrictivos para según qué volumen de negocio o qué tipo de comercio una transnacional podrá demandar

y en el ceta también viene el principio de cooperación regulatoria y el otro día se nos decía

no debería nunca poder pasar por encima de las legislaciones y de los estándares de calidad que ya existen y sin embargo vemos que en el ceta que se empezará a aplicar en octubre ya aparece el principio de cooperación regulatoria como un principio armonizador que devalúa derechos y que denigra libertades

y no estamos haciendo victimismo pero hay una cosa todavía mucho más grave que todo lo que he dicho ya

que no supone demasiada novedad con lo que he venido sosteniendo aquí hay una cosa que se llama la implementación provisional y esa implementación provisional es el cauce de adaptación del ceta a la realidad

esa implementación provisional no necesita de la aprobación por el consejo de la unión europea a través de la unanimidad porque aquí todavía hoy se dice que no nos preocupemos que si el tratado es potencialmente tan malo como algunas y algunos señalamos

pero eso no es del todo cierto se ve con el ceta y por eso traigo a colación el ceta no es cierto

apruebe o se finalice tenga que tener obligado o tenga que llevar acarreado como fórmula de obligación que tenga que ser sometido a validación y consideración por los parlamentos nacionales porque si no por qué no se ha hecho así con el ceta

cuando todavía no está claro ni siquiera si la consideración del ceta es la de un tratado mixto o no para un acuerdo que está negociado desde hace dos años

obligará a que sea avalado o apoyado por los parlamentos nacionales

y hay otra cosa que todavía es más grave porque hasta ahora se decía que en esa fórmula de validación

y que si no se da la unanimidad es decir si un estado miembro decide revocar o

ya no entraría en vigor y eso se nos presenta como el máximo paraguas democrático posible

o no existirá pero qué vemos con el ceta y qué vemos con la

que no requiere voto unánime del consejo que requiere solo voto mayoritario y que por tanto se abre las puertas a que se pueda por la vía de la implementariedad provisional incrustarnos el ttip en nuestras vidas y eso desde nuestro punto de vista desde el punto de vista de eh bildu y no solo de eh bildu cada vez de más organizaciones

la europa social y democrática que en esta cámara se ha invocado muchas veces para hincharse y para sentirse de espíritu europeísta esa de delors y demás

del comercio y para los comerciantes en que se ha convertido la unión europea porque a día de hoy y ese es el problema es que la lex mercatoria la ley del mercado

de los derechos laborales no solo pasa por encima no solo se sitúa por encima los pisotea pisotea todos los derechos los humanos los sociales y los laborales a favor de la lex mercatoria y lo único que le exigimos a este gobierno con esta iniciativa se posicione y lo décimos así abiertamente que se posicione y que lo haga además desde la posibilidad de que todos tengamos toda la información de que recabe información y la difunda de que pase de esa posición de observador a una posición de actor porque no nos vale con que se nos diga con que no hay estudios para ver el impacto que pueda tener la generación de puestos de trabajo o pérdida de puestos de trabajo con que no haya estudios

generar en función de los sectores que se van a crear y también de los que se vayan a destruir genera un mercado más o menos desigual un mercado laboral más o menos desigual más o menos justo o más o menos estable

por ejemplo otras organizaciones como thai center diciendo que va a ser un desastre para las pymes lo que queremos es que se hagan esos estudios

que no tengamos que ser solo nosotros y nosotras quienes traemos este debate continuamente sino que el propio gobierno convencido como pueda estar

presupongo mala actitud en que el ttip pueda ser más factores positivos que negativos lo traiga y lo sostenga y para terminar que haya una consulta a la ciudadanía de este país decimos que lo primero son las personas y que consultar nunca es malo

pues consultemos a la ciudadanía de araba bizkaia y gipuzkoa que tampoco será malo

no va de una confrontación entre los estados unidos de europa contra la unión europea

no va ni siquiera si el comercio es malo o bueno yo acepto que tenga que haber comercio

se imponga los derechos de las personas este es el eterno debate de confrontación de modelos y es el debate entre el capital y la vida digna es el debate entre la obediencia a las transnacionales o la soberanía de los pueblos la soberanía popular y es el debate entre la economía neoliberal con sus tres famosas sectorializaciones de la sociedad

un tercio sobrevive y un tercio se despeña por la exclusión o un modelo donde toda la sociedad tenga todos los recursos para poder disponer de niveles de igualdad de solidaridad y de justicia

sí gracias presidenta señor matute si usted nos dice que tengamos cuidado con lo que se está negociando

y que finalmente el contenido de ese acuerdo nos puede perjudicar estoy de acuerdo con usted efectivamente no podemos mantenernos de brazos cruzados

en relación a lo que se está negociando ahí y evidentemente en función de lo que se termine acordando

posición crítica o no crítica yo creo que en los últimos meses todos los grupos políticos hemos podido explicar cuál es nuestra posición en relación a este tratado que por otro lado todavía no existe

es un tema importante estoy de acuerdo pero ya digo vamos a ver en qué queda y mientras tanto no es que propongamos mantenernos de brazos cruzados sino tampoco tratar de meter miedo a la gente ni ser excesivamente pesimista igual todo acaba bien

son los ciudadanos lo iremos viendo usted en todo caso nos presenta una moción preventiva propone que este parlamento

los estados unidos de américa y la unión europea no sé si rechaza lo que son las simples negociaciones o el hecho de que estas negociaciones sean

sean unas negociaciones ocultas y oscuras lo hemos denunciado e incluso este parlamento así se ha posicionado que negocien nos parece bien

atentos para ver exactamente qué es lo que se está negociando a continuación señala que usted también está en contra de los contenidos que se están negociando yo creo que hay que esperar para ver el resultado y en función de eso tengamos una posición más clara en todo caso ya digo que este parlamento

hemos explicado cuáles son nuestras reivindicaciones y hemos señalado expresamente cuáles son las líneas rojas y qué es lo que no estaríamos dispuestos a aceptar

el debate en la sociedad cosa que todos los grupos compartimos así lo hemos reivindicado la sociedad tiene que conocer qué es exactamente lo que se está negociando y a partir de que se conozca el debate y a partir de ahí también la gente pueda decidir con su voto qué es

defiende y finalmente nos pide que instemos al gobierno a que en caso de una hipotética firma le haga con firmeza lo mismo le digo en función de cuál sea exactamente el contenido pero en todo caso

es muy endeble es poco exigente si usted compara la moción que ha registrado hoy con la transaccional que firmamos todos los grupos el pasado día once de junio de dos mil quince podrá comprobar que la transaccional aquella que firmamos todos los grupos es mucho más exigente y mucho más clara y dice cosas de muchísimo calado por lo menos algunas de ellas se insta a la comisión europea que garantice la debida transparencia durante todo el proceso

evitando el llamado dumping social laboral fiscal y medioambiental

del llamado modelo europeo de bienestar social se habla de respetar escrupulosamente los estándares de calidad europeos se habla de incluso garantizar las propias competencias que nos corresponden como comunidad autónoma

la moción que usted ha planteado nosotros finalmente no hemos presentado ninguna enmienda pero en mente esa transaccional que se registró el pasado día once de junio me gusta más lo que dijo el consejero de empleo durante la interpelación me pareció que todo lo que dijo fue perfectamente razonable que su posición

con el señor donald trump me parece mucho más razonable lo que pude leer al consejero me parece mucho más razonable también lo que propone

transaccional que se aprobó hace un año estaríamos de acuerdo con el acuerdo en el caso de que este acuerdo finalmente se acuerde si

es bueno para el conjunto de la sociedad si no lo denunciaremos pero es que esto es algo que ya lo estamos planteando en las diferentes instituciones donde tenemos representación cuáles son las líneas rojas cuál es el estado del bienestar que queremos proteger

etcétera creo que los diferentes partidos políticos estamos en general a la altura de las circunstancias es decir no somos tan bobos como para dejarnos engañar tan fácilmente quiero decir luego estará la posición política de cada uno pero ya digo compartiendo su preocupación en relación al asunto

si finalmente hay acuerdo este acuerdo sirva para mejorar la vida

por una europa social y democrática por encima de todo lo demás en ese sentido el mercado también puede ayudar porque sin mercado
no hay libertad y seguramente tampoco hay democracia eskerrik asko maneiro jauna

señor matute nos vuelve a traer un debate falso usted no está en contra del tratado trasatlántico del ttip no está en contra ni los demás estamos a favor

no existe entonces no venga aquí a plantearnos cosas que no existen

no nos venga usted a decir que es que usted está a favor del comercio

el otro debate que tuvimos cuando lo tuvimos la otra vez ya le dije hombre si fuera con putin como es su héroe entonces sí valdría

con razón del embargo económico de estados unidos a cuba

sí porque a ustedes les parecía muy mal

eso era el embargo al parecer a ustedes les parecía muy bien que estados unidos comerciara con cuba digo yo no

entonces nos ponemos en contra claro

liberalizar el comercio internacional es bueno o es malo cuando nos ponemos contentos porque nuestras empresas exportan mucho

nos parece bien cuando el grupo mondragón exporta mucho nos parece bien nos parece mal

queremos que exporte más que cree más puestos de trabajo cuál es su planteamiento y vamos a dejar de hablar

el primer tratado de libre comercio en el que nosotros entramos fue en la unión europea es malo nos salimos

sea un poco coherente todos esos males que usted decía que vienen con estos tratados oiga el primero el de la unión europea nos salimos

por qué no es medianamente valiente y dice sí me quiero salir nosotros planteamos salirnos por qué disimula si ese es el fondo de la cuestión sí claro ese es el fondo de la cuestión por qué los países más ricos del mundo

el ranking de comercio internacional entre los que están todos esos que usted le parece tan mal suecia alemania noruega japón canadá estados unidos reino unido finlandia nueva zelanda nosotros no estamos estamos

esos sí están por qué se oponen siempre los que viven de la subvención

que llevan décadas oponiéndose a que en europa por ejemplo los países africanos

esos que están llenos de multinacionales y de tíos riquísimos puedan exportar a europa sus productos

lo he tenido yo hace ya mucho tiempo claro y usted también se oponía a eso sí sí porque claro son los ricos del mundo

todo el mundo sabe se lo han dicho cuarenta veces que este tratado es muy complicado se lo dijimos ya hace tiempo es muy complicado que salga sabe por qué

porque todos los parlamentos europeos lo tienen que ratificar y aunque en el sur de europa

más aceptación popular tiene porque es donde más paro hay el país más entusiasta con este tratado es grecia seguido de españa

con más del sesenta por ciento y sabe usted qué país es el que menos gracia le hace hay dos

usted cree de verdad que una multinacional americana o europea tiene problemas para trabajar en américa o en europa

o tienen más problemas las pequeñas y medianas empresas a la hora de exportar y adecuarse a los parámetros que se les exigen en cada uno de los sitios usted quién creen que tiene más problemas la multinacional de verdad

multinacional que no trabaje en europa hoy hoy que no nos esté vendiendo sus productos hoy conoce alguna sí

hombre yo qué quiere que le diga es que me salga usted ahora defensor de nuestra legislación laboral oiga encantado bienvenido al club

internacional que es que nos va a menoscabar los derechos que tenemos verdad con nuestra legislación laboral esta tontería suya

hace también hace ya más de un año claro oiga entrar en la unión europea significó

pues no pues no pues no entonces no venga metiendo diciendo no sé qué cosas que no son verdad ni van a ser verdad en ningún caso luego hay algunas cosas que

además por lo visto nosotros los europeos somos fantásticos y los americanos y canadienses son unos pobres muertos de hambre que les engaña todo el mundo

ha criticado mucho con esto de homogeneizar criterios por ejemplo y le voy a poner ejemplos concretos

las maquinas de pastelería europeas no se pueden vender en estado unidos sí en el resto del mundo

los criterios sanitarios americanos y las ostras europeas no se pueden vender en estados unidos

sobre la propia ostra para ver si esta buena mientras que en europa se hace sobre la calidad del agua a usted le parece mal homogeneizar criterios

en esos dos ejemplos que le estoy poniendo y en cualquier caso le diré mire yo creo que esto fue una oportunidad que hubo en la época de obama estados unidos lo planteó en la época de obama a europa

asia y ya lo tienen en marcha pero tengo que reconocerle que usted tiene unos

y probablemente no saldrá ningún tipo de acuerdo

tenga usted en cuenta que coincide con gente que ha ganado las elección en francia

y por lo tanto además perdón sí sí con los mismos

exactamente con los mismos argumentos con los mismos argumentos que usted ha dado hoy aquí los mismos la misma campaña la misma campaña

pero también tiene otro socio que es un señor donald trump que a lo mejor dentro de poco es presidente en estados unidos que literalmente ha dicho que apuesta por retrasar las firmas como los pactos del ttip y tumbar el pacto de comercio que tiene hoy con canadá

por lo tanto con estos socios y en fin tal y como vemos las cosas en alemania dudo mucho que los europeos lleguemos a tener un tratado

entre otras cosas porque parece que los intereses de otros siempre particulares van a primar en contra del interés general

sí gracias presidenta consejero buenos días el grupo socialista señor matute no comparte los objetivos que usted plantea en su moción porque en definitiva lo que se está diciendo a priori es que se rechacen las negociaciones y en última instancia

y los socialistas vascos en cambio no rechazamos las negociaciones entre la unión europea y estado unidos y sí consideramos positivos llegar a un acuerdo pero no a cualquier acuerdo

una serie de líneas rojas que marcan los límites inviolables de la negociación entre europa y estados unidos

en el pleno como en comisiones de la asociación transatlántica de comercio e inversión entre la unión europea y estados unidos y es curioso que este tema

vasco cada vez que hay una campaña electoral pasó con las elecciones europeas pasó con las elecciones municipales y forales del año dos mil quince y ahora estamos ya en la precampaña

y está claro que este tratado es el acuerdo comercial más importante que tendría lugar entre la unión europea y los estados unidos y con un impacto económico de gran calado que no voy a explicar hoy porque ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones

en muchos ámbitos es por lo que las negociaciones no son fáciles no son sencillas y de ahí que desde el año dos mil trece hasta hoy se hayan realizado trece rondas de negociaciones

y es cierto que algunas de las críticas realizadas a la forma de llevar acabo las negociaciones sobre todo la falta de transparencia han sido verdad y han sido efectivamente un error el mayor error que pudo cometer la comisión barroso fue el secretismo

la política informativa de europa y del gobierno de españa respecto a las rondas de negociaciones

lo que es una torpeza política cuando la información se hace imprescindible para dar respuestas a las preocupaciones ciudadanas y poder tener un debate serio y riguroso

en la que se establecen las líneas rojas a esas negociaciones sobre el acuerdo y así en referencia a la transparencia la participación de la sociedad civil y la difusión pública y política se recoge en esa resolución todo un epígrafe que plantea aumentar la transparencia de las negociaciones aplicando las recomendaciones del defensor del pueblo europeo en particular las relativas a las normas de acceso público a documentos

de los eurodiputados a todos los documentos promover un compromiso aún más estrecho con los estados miembros para garantizar un amplio debate público basado en hechos y en honor a la verdad en los últimos tiempos es verdad que se han desclasificado documentos

y si son importantes las formas más aún lo son el fondo y el contenido de las negociaciones y por eso a los socialistas nos parecen claves las propuestas de esa resolución del parlamento europeo del ocho de julio sobre los límites de la negociación

yo destacaría de entre ellas las que aluden a los derechos de los trabajadores a riesgo de los servicios públicos al arbitraje privado y a otras cuestiones como la cláusula status quo o trinquete

la protección de datos y la diversidad cultural y lingüística que algunas de ellas usted ha mencionado señor matute sobre los derechos de los trabajadores este era y es un punto innegociable para los socialistas ningún tratado de europa con ningún otro país puede pasar por encima de los derechos laborales de nuestros trabajadores

se reclama a los negociadores la inclusión de un capítulo de sostenibilidad ambicioso de obligado cumplimiento y plenamente ejecutable que tenga como fin la plena ratificación

de la organización internacional del trabajo y de la agenda de trabajo decente de la oit se recoge también la necesidad de garantizar asimismo que la aplicación de las disposiciones laborales

estén sujetos a un proceso de seguimiento eficaz en el que participen los interlocutores sociales y representantes de la sociedad civil y al mecanismo general de solución de diferencias

la exclusión de los servicios de interés general y los servicios de interés económico general actuales y futuros entre otros agua salud servicios sociales sistema de seguridad social y educación que se excluyan del ámbito de la aplicación de este acuerdo a fin de garantizar

y cuando proceda las locales sigan teniendo pleno derecho a introducir adoptar mantener o rechazar cualquier medida relacionada con la puesta en marcha de la organización

conforme a lo previsto en los tratados y en el mandato de negociación de la unión europea esta exclusión se aplicará con independencia de cómo se presten y se financien dichos servicios

en la resolución se plantea sustituir el mecanismo de resolución de litigios entre inversores y estados

que esté sujeto a los principios y el control democráticos en el que los posibles asuntos sean tratados de forma transparente por jueces profesionales independientes

en el que se garantice la coherencia de las decisiones judiciales se respete la jurisdicción de los tribunales de la unión europea y de los estados miembros y que los intereses privados

los objetivos en materia de políticas públicas y en septiembre de dos mil quince los socialdemócratas europeos introdujeron en la comisión un nuevo modelo para resolver litigios del que lo más destacable para ser breve es que habrá jueces y no árbitros

directa y conjuntamente por la unión europea y el país socio con el que se cierre un acuerdo comercial y de inversiones la comisión europea contempla quince jueces en el tribunal de inversiones

ni trabajar como abogados en casos de disputas y se pretende además la publicación de todos los documentos en línea para sean accesibles al público la resolución plantea también la cláusula

se excluyen los servicios de interés general el agua la salud la educación esos servicios actuales y futuros y también los servicios de interés económico general independientemente de cómo se financien y se exige a la comisión la garantía de la capacidad de los gobiernos para recuperar la titularidad de un servicio y la potestad

y discriminatorias injustificadas en contra de los inversores extranjeros y la resolución de julio del dos mil quince

el respeto pleno de los sistemas normativos establecidos a ambos lados del atlántico y el papel del parlamento europeo y su control democrático en los procesos de regulación de la unión europea y se preserva plenamente

de las autoridades nacionales regionales y locales de legislar sobre sus propias políticas en particular las políticas sociales y medioambientales estas son las líneas rojas algunas de ellas porque todavía tenía más pero no me va a dar tiempo

lo ha aprobado el propio parlamento europeo esto no son bondades que algunos grupos políticos se nos puedan ocurrir sino que son realidades líneas rojas ya que marcan determinadas negociaciones por tanto es importante es un paso

de esa resolución del parlamento europeo que hacen además frente

más importantes que se han venido planteando y que coinciden en gran

y con inquietudes que también tienen los socialistas españoles europeos y cómo no vascos es verdad que esta resolución nos proporciona mayor tranquilidad

al menos no estaremos al margen de ninguna expectativa estaremos controlando porque entendemos que no se puede aceptar

y ningún acuerdo que suponga un paso atrás ni en estándares europeos de protecciones medioambientales ni en estándares europeos de derechos sociales y laborales y

pasado del año dos mil quince en este parlamento y las cinco determinaciones que venían en esa enmienda transada están en absoluta y en total coherencia con todas las determinaciones de las líneas rojas que ha aprobado el parlamento

ni de modificarla porque entendemos que lo que hay que hacer es desarrollarla y por tanto no hemos presentado ninguna enmienda a su moción señor matute

señor matute su objetivo no es pedir hoy la posición ni la opinión de los grupos parlamentarios vascos sino su opción al menos y su planteamiento es que se rechacen las negociaciones que se rechace el acuerdo a priori por lo tanto entendemos que ese acuerdo sería beneficioso si viene

con esos condicionantes que le he planteado que son algunos de ellos tiene veintiuno páginas la resolución del parlamento europeo y por lo tanto

el caso es que tenemos líneas rojas que prohíben determinadas cuestiones por si pudiera servirle

el debate pero para subrayar la importancia que tiene el comercio y el comercio internacional le puedo señalar señor matute que el primer tratado

firmado por una institución vasca se produjo y fue firmado

con inglaterra esa institución que firmó ese acuerdo fue el territorio foral de gipuzkoa y se produjo además después

que los mismos actores habían sido protagonistas en mil cuatrocientos setenta y cuatro si tengo tiempo luego ya le hablaré

en este caso del año mil novecientos cuarenta y cuatro de su filosofía

yo creo que el comercio internacional lo debemos tomar también como un antídoto para evitar proteccionismos comerciales determinados controles que nos pueden llevar a determinadas situaciones de autarquía y que pueden ser como

la chispa de guerras incluso guerras mundiales

al margen de otro tipo de interpretaciones por parte de los que se oponen al tratado a que se negocie es unas actitudes de cierto complejo

y de cierto miedo y de cierto antiamericanismo por principio

yo la verdad es que europa desde un punto de vista nominal

estados unidos es la primera economía del mundo estados unidos nos supera en numerosos parámetros eso es evidente pero potencialmente europa y nominalmente también es más fuerte que estados unidos por lo tanto nosotros pensamos que hay que darle la vuelta a la visión que se tiene de este tipo de acuerdos y de negociaciones

porque para nosotros esto tiene que representar una oportunidad para europa y para euskadi tiene que representar una oportunidad la negociación y la firma de este acuerdo

y explicar con claridad el estado actual de la cuestión sin caer en falsedades y determinados mitos y miedos porque vamos a ver es

para que los estándares europeos marquen referencias a nivel global

quiero decir señor matute entre las economías y las democracias más abiertas del mundo tenemos la oportunidad de colocar como referencia nuestros estándares y evitar una degradación de las condiciones en la línea que marcan algunas de las potencias emergentes se trata de verlo

pero bueno le puedo hacer referencia a la carta oficial que nos remitió la oficina de la comisión europea en madrid donde en el último párrafo dice que la comisión no considerará en el marco de esta negociación ninguna disposición que pueda dar prioridad a objetivos puramente comerciales o de eficiencia económica

en materia de salud pública medioambiente consumidores o de protección laboral que se encuentran recogidos en la legislación europea es una carta oficial me imagino que usted la tiene pues está en la página web de la comisión europea firmada por el señor owen donde afirma

sobre euskadi ya se le ha dicho que las multinacionales realmente no necesitan de este tipo de acuerdo para poder operar y que si esto beneficia a alguien precisamente a las pequeñas y medianas empresas que son aproximadamente un ochenta por ciento de las empresas en europa y también en euskadi en euskadi y en toda europa

si le puede servir el país vasco es la tercera comunidad autónoma exportadora a estados unidos en los últimos cuatro años estados unidos ha sido el tercer destino de las exportaciones vascas

y octavo en origen de las importaciones en fin hay toda una serie de datos
y estudios hechos sobrequé sectores podrían verse beneficiados amaitzen joan uribe etxebarria jauna bai berehala pero yo

un aspecto también en este sentido yo creo que este acuerdo si es un buen acuerdo y para eso lo vamos a seguir y creemos que hay una serie de garantías políticas que lo tienen que hacer así va a ir en la línea del fomento

defendemos para la economía vasca en general para nuestro sistema productivo y para las empresas que son los vectores de la innovación y la internacionalización y son dos vectores íntimamente ligados porque la internacionalización supone

de la internacionalización que tiene que incorporar innovación se traslada a toda la cadena de valor y los empleos son más seguros y los salarios

eskerrik asko presidente andrea no se preocupe señor uribe etxebarria que tras agotar la prórroga no había penaltis

forzando al límite comentarle una sola cuestión

no creo que tenga más sentido que el debate sea bronco que que pueda ser así y podamos exponer lo que se ha dicho pero hay una cosa que desde luego

usted hablaba de que a las multinacionales y a las transnacionales no les interesa este acuerdo dígales que dejen de gastar pasta inútilmente

las trece rondas de negociación que ha habido con un noventa y cinco por ciento de reuniones presenciales por parte de transnacionales y solo un cinco por ciento por parte de organizaciones sociales o sindicales digo yo que para no interesarles están haciendo de mecenas demasiado tiempo

lógicas irracionales que nos mueven a algunos para mantenernos en los mitos pero no parece

en la comisión pues también para que sirva para desmontar mitos yo no pienso que todas las personas del pnv sean de derechas lleven el jersey anudado al hombro y tenga que pensar no sé qué cosas créame que no quien me conoce en su bancada igual usted no pero quien me conoce en su bancada

entendamos los límites del debate que yo defienda mis posiciones con intensidad y que además me las crea no significa

y que defienda mis posiciones con intensidad es algo muy diferente que que cambie mis posiciones en función de la intensidad que al gobierno le interesa porque de verdad que uno cae en el histerismo ahora no me estoy dirigiendo a usted estoy mirando para allá porque está ahí toda la bancada además en cualquier caso como no va a tener derecho a alusión como no me lo han dejado a mí antes

como le decía una única cuestión más

que no me mueve el antiamericanismo que lo he señalado en mi primera intervención igual lo llevaba escrito y no le ha dado tiempo a corregirlo que lo que me mueve es una lógica de confrontación con un modelo que consagra el mercado por encima de los derechos de la gente

que la necesidad de cambiar el marco económico para llevarlo a un marco del lex mercatoria

es necesario en ese contexto esa es su opinión yo la tendré que respetar la combatiré dialécticamente y punto

que es que en canadá y en estados unidos están protestando también contra este tratado

de la leche es decir que tengo de aliado a donald trump que tengo se ha equivocado en una cosa y esa se la corrijo ahora que es lo que intentaba decir y usted seguía elevando el tono pensando que le estaba diciendo no sé qué cosa no es jean marie le pen el histórico líder del frente nacional de la extrema derecha francesa quien ganó las elecciones fue su hija marine le pen a jean marie le pen lo echó la hija del partido

otras cuestiones y sobre otros temas quiero decir que las vinculaciones emocionales y las creencias ideológicas se llevan hasta donde uno quiera

es que sus propios consejeros dos la señora tapia y el señor toña ya han reconocido que es que ha sido bastante opaco que ha sido muy opaco por no decirlo de otra manera no quiero ir más allá en lo que ellos han dicho es decir no parece que haya habido transparencia

sea de lo que estamos hablando que de lo que estamos hablando es de hasta que no habido filtraciones

variable que están teniendo diferentes tendencias políticas europeas tiene que ver con las preocupaciones que les está entrando cuando se conoce lo que están negociando esa es la realidad que estamos viviendo

una última cuestión con respecto a los sectores excluidos aquí es el eterno debate sobre si los sectores excluidos

yo sé y voy conociendo cuál es la posición de la socialdemocracia europea o de los partidos socialistas europeos

del que se quieran reclamar lo que también deberían de decir es cuál es la posición que van a sostener con el tisa

líneas rojas que están estableciendo se caen se caen porque el tisa es el que afecta

y porque no es lo mismo decir que se van a garantizar determinados servicios que pueden no estar mal con que no se diga que no se van a remunicipalizar o que se va a prohibir remunicipalizar algunos que ya han sido privatizados que se está diciendo en el tisa y que consagra en el ceta

por parte de nadie lo único ya para terminar porque el debate da para lo que da

qué le parecerá no sé si le preocupará más que las ostras o menos o si de la combinación de ambas usted entiende que sale ganando o sale perdiendo mi legislación laboral marco son el estatuto de los trabajadores ninguna de sus reformas laborales que han sido un atentado contra los derechos de los trabajadores y si fuera cierta mi conexión con putin con china con donald trump y con no sé quién también bernie sanders y también con

señores socialistas aquí presentes si mi conexión con todo eso fuera cierta si mi poder

y entregar las armas en esta posición eskerrik asko matute jauna

muchas gracias señora presidenta señor matute no sé si vivimos en mundos

pero casualmente siempre coinciden la extrema derecha y la extrema izquierda

coinciden tanto que en grecia gobiernan juntos coinciden tanto que en francia

coincide con la extrema izquierda en este tema y coinciden tanto que incluso en estados unidos sabe usted quién coincide

por eso le digo que usted coincide con gente muy importante y que probablemente

nunca lleguemos a poder votar este tratado este tratado que podía ser una buena oportunidad o no o no lo que es un poco

raro y no sé si es por lo de los mundos paralelos mire yo no conozco a nadie

voluntariamente para salir peor yo no sé si su experiencia en bildu eso le ha ocurrido

y por eso como viene de este mundo paralelo lo coge y nos lo traslada aquí

y ve que va a ir mal dice pues no negocio no firmo y se acabo la historia pero usted por lo visto no tiene una experiencia paralela distinta distinta y por eso nos plantea que es mejor no sentarse a negociar eso es lo que nos está planteando aquí

a lo mejor nos va muy bien a lo mejor se crean puestos de trabajo luego tenemos una proposición

sobre el empleo juvenil pues a lo mejor esto era una oportunidad para que nuestras empresas pudieran crear más empleo para esos jóvenes

negocian tan mal siempre y luego firman y pierden esa es su experiencia política personal etcétera yo

cuando le ofrecen una oportunidad que también le digo que se va a acabar

eso está claro y cuando precisamente los que más se oponen y en europa son los países que más multinacionales tienen los que más multinacionales tienen alemania

austria bueno de gran bretaña ni vamos hablar porque igual están ahí con el brexit

ellos igual lo hacen aparte yo no sé por qué

ustedes no quieren hacerlo salvo que su política consista en todo cuanto peor mejor no hay que intentar hacer nada

para ustedes supongo bueno se me ha olvidado tienen aquí sí que tienen otro socio que son los de podemos que también están en la misma historia pero bueno las extremas izquierdas evidentemente coinciden ahí les falta aquí en españa encontrar un partido no no ya ve que no coincide conmigo les falta encontrar todavía su homónimo

para que puedan sentirse plenamente identificados muchas gracias

sí gracias presidenta yo creo que el debate está

la moción porque señor matute ni usted ha venido predispuesto a que le convenzamos de nada ni siquiera que le planteemos ninguna enmienda

rechazar las negociaciones y rechazar el propio acuerdo era su exigencia

yo he venido aquí a explicarle que entendiendo que puedan existir amenazas o que el acuerdo

para europa el acuerdo realmente hay indicios de que el parlamento europeo no se va a dejar colar por la puerta de atrás cuestiones que usted

la enmienda que hicimos y que aprobamos en junio del año pasado aquí en este parlamento está en la misma sintonía y tiene la misma coherencia que las consideraciones y recomendaciones y líneas rojas que ha marcado el propio parlamento europeo en julio también del año pasado el ocho de julio y yo creo

lo más importante y lo que puede dar tranquilidad seguridad certeza no pero evidentemente nadie

sin controlar sin vigilar sin estar expectante este acuerdo

tiene de impacto económico en las economías sobre todo en la europea y por lo tanto seguiremos estando

creyendo que lo mejor sería llegar a un buen acuerdo pero como le decía antes no a cualquier acuerdo sí a un buen acuerdo con el respeto a los derechos y a los estándares europeos que hemos alcanzado en materia social en materia laboral en materia de servicios

hombre le entraban dudas respecto a la posición de los

va por otro camino y yo lo que le diría también se lo comentaron hace una semana en esta misma cámara el tisa se puede convertir en la puerta de entrada de muchos de los graves problemas

y por lo tanto tendrá que tener un tratamiento adecuado

así lo hagamos llegar a las instancias donde realmente se marcan esas líneas y esos considerandos en las negociaciones y por lo tanto si con el ceta no ha ocurrido es porque nadie se preocupó o muy poco se preocuparon de darle

que tenía el ceta cuando sí se le ha dado al ttip y ya se han marcado las estrategias que a mí es lo que me parece que es lo importante

quizás eso ha venido bien para este para el ttip y tendremos que estar vigilantes con el tisa sile apetece y le da tiempo

bai eskerrik asko presidente andrea bueno para seguir un poco

a colación una anécdota mil novecientos noventa y cuatro

el año en que se inauguró el eurotúnel en aquella ocasión porque tampoco es que sea una novedad también existían encuestas y existían determinados mecanismos de participación de los ciudadanos en torno a múltiples cuestiones entonces había algunas encuestas que se realizaron en el sur

territorio de mucha prosperidad y había no una persona sino más de una persona

y cuando se les preguntaba la razón por la cual estaban en contra decían

nos van a invadir aquí en el reino unido todas las ratas del continente es decir que a nivel de mitos miedos

no sé el abanico es muy amplio y yo sí que pido en ese sentido un voto de confianza a las negociaciones a los controles que tienen que tener esas negociaciones

a la propia europa bueno yo no me voy a extender entre la extrema izquierda extrema derecha a mí me quedan algunos nombres pues también hay algún que otro polaco

demagógica porque yo sabe que le conozco de hace mucho tiempo y

pero yo aprecio su capacidad reflexiva y creo que no

determinados argumentos al tuntún por eso y en ese mismo tono sí que si le sirve de dato de reflexión

que hay partidos políticos y líderes políticos de la extrema izquierda y de la extrema derecha

pero le voy a hacer un guiño también en algo que a mí también

me lleva a la reflexión y es que hace aproximadamente dos años en parís se presentó quizá usted lo conozca el manifiesto por una democracia global estaban pascal lamy que fue jefe de gabinete de jacques delors

etcétera y venía a decir o venían a proponer el impulso de la democracia global promoviendo la existencia de instituciones democráticas a nivel continental

iba con el reloj atrasado en relación a la economía y que la economía se ha globalizado pero las instituciones políticas y la democracia no en definitiva lo que estaban defendiendo y eso es yo creo que motivo de reflexión es una democratización

o bien una globalización de la democracia porque el orden actual provoca evidentemente desequilibrios y algunos de ellos graves porque una economía global quizás todos lo tengamos que reconocer

no meros acuerdos intergubernamentales que son en muchas ocasiones frágiles fragmentados y que esas instituciones

ocuparse en la no proliferación de armas en la equidad y en la sostenibilidad y ser eficaces y democráticas y si son democráticas sin ningún tipo de complejo también aquí euskadi tendría que tener su lugar yo le echo un canto e intentar

a estas negociaciones en favor de europa una europa que sabemos perfectamente que está en crisis pero precisamente puede ser una oportunidad y puede ser una oportunidad porque lo que le decía antes nominalmente europa es más fuerte es más grande nominalmente que estados unidos

no hay ninguna europea nos dice algo el hecho de que en esas diez empresas que son todas estadounidenses las tres primeras sean apple google y microsoft y que la sexta y la séptima sean facebook

primeras empresas eran japonesas hoy no hay ninguna y de las ciento treinta y uno empresas de reciente creación gracias al capital riesgo

ochenta y cinco de las ciento treinta y uno ochenta y cinco están en estados unidos

y tan solo trece en europa con esto lo que quiero decir es que este acuerdo comercial puede reforzar a europa porque hay una gran revolución en marcha que es la revolución digital y europa se está quedando atrás

es perfectamente comparable a lo que fue la revolución industrial pero con un elemento

meteórica con la que está evolucionando para terminar le iba a hacer algún tipo de referencia a las empresas vascas lo he hecho en la primera intervención pero